lehendakari no esté hoy en este debate un debate importante y que haya decidido cruzar el charco

creo que hubiera venido bien sobre todo teniendo en cuenta que es el gobierno de las personas estar

es la segunda vez que este grupo presenta una interpelación en esta legislatura en relación a este asunto

interpelación también motivó una moción en la que salió un acuerdo que este grupo se abstuvo por considerar insuficiente berriro ere talde honek

se llegó a un acuerdo en el que este grupo se abstuvo por considerarlo insuficiente por una parte este gobierno

dicha evaluación se trajo en el plazo de dos meses que es lo que fijaba el acuerdo por otra parte también

la remisión instar al gobierno a la remisión de una estrategia

tengo que recordar que ya el lehendakari en el pleno de política general del dos mil quince

quiero recordar también aquí que los anteriores consejeros de empleo y políticas sociales

y tengo que decir aquí también que la consejera también se comprometió y dado que se está en un proceso de reflexión a traer esa

pasados ocho meses vemos que no tenemos esa estrategia de familia también tenemos que decir que el propio lehendakari en un acto preelectoral

una inversión de doscientos millónes de euros a la citada estrategia señorías el no tener todavía aquí una estrategia

cuando ya como digo el lehendakari nos hablaba en el dos mil quince de que estaba próximamente para llegar que incluso

de que había un borrador supone que la promesa del lehendakari no está siendo cumplida no se está cumpliendo

se trae como dijo la consejera en la interpelación en el primer trimestre del dos mil dieciocho pues las consignaciones presupuestarias vinculadas a la citada estrategia de familia no las veremos

hasta el presupuesto del dos mil diecinueve digo en el mejor de los casos por lo tanto creo que estamos hablando de algo que se está demorando y para nosotros de forma injustificada sabemos que ya hay un posible borrador que se están realizando

asociaciones pero como digo esta estrategia para nuestro grupo llega tarde y a parte de la importancia de la estrategia porque va a marcar

en el país vasco durante los próximos años de dicha estrategia deriva el plan

y hay que señalar que también llevamos un considerable retraso en que el gobierno remita

a este parlamento el anterior plan de familia acababa su vigencia

dos de noviembre de dos mil diecisiete no tenemos

pues no puede estar y en el mejor de los casos si la estrategia llega según los compromisos de la señora consejera en el primer trimestre pues el plan

es decir para nosotros para el grupo popular

una prioridad y nosotros queremos denunciar nuevamente en esta desde el partido popular la inacción de este gobierno la falta de decisión con el impulso un impulso decidido de las políticas de familia en nuestra comunidad en la evaluación

iniciativa del partido popular se señalaban datos muy preocupantes pero datos muy preocupantes que ya se señalaban en el informe extraordinario del ararteko de dos mil catorce

de la situación de las familias vascas por lo tanto creo que ya había suficientes alertas en los datos de los sucesivos informes que se han realizado estudios encuestas para saber que la política de este gobierno del gobierno del señor urkullu necesitaba un cambio en la materia

anterior nos decía que la natalidad había bajado en el año dos mil quince un dos coma ocho por ciento en el año dos mil dieciséis un dos coma uno por ciento

que la natalidad bajaría en el periodo dos mil dieciséis dos mil veinticinco un veintidós por ciento

el envejecimiento de la población si a esto le unimos el aumento de las personas dependientes creo que tenemos un problema estructural en relación a las políticas de familia vinculadas a las bajas tasas de

el alto grado de envejecimiento y de dependencia de nuestra población que requiere soluciones efectivas soluciones concretas soluciones

no vemos por parte de este gobierno en relación a seguir poniendo deberes a este gobierno

azalduko dut en el texto de la moción en un primer punto instamos al gobierno vasco a elaborar y remitir antes de la finalización del periodo de sesiones

es decir la consejera nos habló del primer trimestre de dos mil dieciocho creemos que hay que adelantar ya la remisión

y que se elabore y se remita por tanto al parlamento vasco antes de que finalice este periodo de sesiones es decir antes de diciembre de dos mil diecisiete

interinstitucional de apoyo a las familias como deriva ya el señalado del plan estratégico

y por otra parte un punto que nos parece absolutamente imprescindible y que esto

con los grupos que apoyan al gobierno por ahora señora presidenta no hemos llegado a un acuerdo pero dado que hoy tenemos también la oportunidad de votar al final de la sesión

podamos llegar a un acuerdo planteábamos el incrementar un cincuenta por ciento las ayudas a las familias con hijos e hijas descendiéndola progresivamente de dos a tres años las ayudas económicas por el segundo hija e hijo esto es algo

un tanto insuficiente es un avance pero creemos que en un periodo

este gobierno puede avanzar mucho más en políticas de familia en ayudas cuantías

ayudas por eso también planteábamos incrementar las ayudas de los terceros hijos y sucesivos tanto en su cuantía como en su duración y esperemos que llegar a un acuerdo por otra parte también hacemos referencia en uno de los puntos a algo acordado en los presupuestos que tiene

que es la reducción del siete por ciento prevista en las leyes de presupuestos del ejercicio dos mil doce hay que señalar que en un escenario muy concreto de recesión económica se rebajaron las cuantías tanto de las ayudas conciliación

para las familias el ejecutivo del señor urkullu que tanto denunció

cuatro años no incrementó o no eliminó esa

y nosotros hemos considerado oportuno como grupo popular también incorporar esa previsión en el acuerdo presupuestario que materializamos el año pasado y que hace referencia a que esta disminución se producirá de forma progresiva

sucesivos por lo tanto estos son los puntos que consideramos imprescindibles abordar en un debate de estas características cuando hablamos

creemos que en este momento es importante que se remita ya a esta cámara la estrategia de familia e infancia creemos que ya es importante también e indemorable

interinstitucional de apoyo a las familias creemos que ya se debe de materializar y que ya hay que

en relación a esta cuestión para que se materialice de una vez por todas ya el incremento de las ayudas en una anualidad de dos a tres años por el segundo hijo y también que ya de una forma indemorable se aborde también el incremento de las ayudas a los terceros

los problemas que tenemos en este momento en la natalidad indudablemente las ayudas no son suficientes pero sí que hay que decir

se hace una valoración muy positiva de estas ayudas y hay porcentajes muy amplios de la sociedad vasca que consideran

deberían de incrementarse para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y también para apoyar a las familias a tener hijos e hijas

de abordar entiendo que hay posibilidad de llegar a un acuerdo pero sí que nosotros como grupo popular exigimos un mayor compromiso a este a los grupos que apoyan al gobierno al partido nacionalista vasco y al partido socialista creemos que es hora de ir ya mucho más allá de las meras palabras y de las letras que se ponen en los programas electorales o en el propio programa de gobierno y por eso espero que ese

en un acuerdo en los términos que ha anunciado este grupo por eso señora

presentar una transacción en los términos que he anunciado en relación a la moción planteada besterik gabe eskerrik asko

en la moción del pasado nueve de marzo porque entendemos que este debate vuelve a ser el mismo

hoy al igual que entonces reafirmamos nuestro apoyo a las ayudas a las familias tanto por nacimiento adopción como especialmente las destinadas a la conciliación vamos a defender la necesidad de que las ayudas económicas se le sumen también otras políticas que aseguren que todas las familias y las personas que las integran puedan desarrollar vidas plenas no podemos compartir la iniciativa del partido popular porque solo promueve

consideramos que es insuficiente parece que en el fondo no quieran abordar realmente las causas que motivan que muchas personas o muchas familias

sus necesidades la parlamentaria del grupo popular mencionó en la interpelación de febrero luego en la moción de marzo hace dos semanas en la interpelación y también en la intervención de hoy

de acuerdo pero no ha destacado alguna de las conclusiones y recomendaciones que nosotras consideramos que también son importantes por ejemplo

el escaso y tardío desarrollo de las políticas de conciliación de la vida familiar laboral y personal en un marco profesional de gran dedicación horaria el necesario apoyo a la familia en situación de vulnerabilidad o la falta de transversalidad en el discurso estamos de acuerdo

que solucionen algunos de estos problemas pero es que además en otras iniciativas y debates nos encontramos con propuestas de su grupo parlamentario que no hacen más que recortar derechos subjetivos

pero no solo eso es que además suponen respecto a nosotras una diferencia de fondo de planteamiento y de visión sobre cómo

y como ejemplo evidente su postura en relación a la renta de garantía de ingresos una postura que pone en riesgo

de vulnerabilidad de las que usted solo se acuerda en el discurso o solo se acuerda de una parte de ellas

como si no fuera igualmente injusto para ellas la reducción extraordinaria del siete por ciento hoy al igual que en marzo parece que su grupo parlamentario pudiera llegar a un acuerdo con nacionalistas y socialistas vascos no vamos a decir que no hayan hecho ustedes todo un esfuerzo

y no lo hemos conseguido porque cerrar este acuerdo o esta propuesta para nosotras supondría cerrar la posibilidad de un debate más amplio y profundo sobre las causas que motivan las dificultades de tantas familias en euskadi

consideramos que las propuestas que hoy se ponen sobre la mesa reeditarían un acuerdo que no deja de ser una tirita para un problema estructural y de fondo

definiremos nuestra posición de voto desde elkarrekin podemos junto con eh bildu a quien agradecemos la disponibilidad para llegar a un acuerdo proponemos lo mismo que ya decíamos en marzo porque apoyar a la familia implica diseñar e impulsar política desde una visión integral

con el conjunto de las prestaciones económicas y siempre incorporando la perspectiva de género y diversidad como elementos que deben estar presentes todos ellos porque se puede impulsar la mejora de ciertas ayudas económicas y es innegable que eso supondría un avance pero si esto debilita el sistema de garantía de ingresos

y la conciliación o no se impulsan de forma clara políticas para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda

o para poder decidir libremente sobre cuál es el futuro que quieren

lo hace por dificultad de acceso a una vivienda por cuestiones económicas o por cuestiones laborales un ejemplo claro es el porcentaje de familias monomarentales en riesgo de exclusión social la feminización de la pobreza y la infantilización de la misma son dos fenómenos estrechamente ligados que tenemos que abordar pero también en euskadi hay una diversidad de arreglo familiares que no encuentran reconocimiento ni apoyo en las instituciones

la conciliación recae en particular sobre las mujeres las que directamente acaban asumiendo la práctica totalidad de las labores de reproducción cuidados y del hogar

salto mortal no sabemos cuál es el acuerdo al que van a ser

proposiciones que han planteado tanto el grupo proponente como los grupos que sustentan al gobierno esta variante

es necesaria una mayor implicación desde lo público un sector público potente y un cambio radical en los derechos laborales y sociales creemos que algunas de estas cosas nos separan de algunas de ustedes

desde luego que vemos la necesidad de impulsar un pacto para abordar las políticas un pacto en el que no busquemos réditos sino en el que busquemos acuerdos y mejoras integrales

opinión de elkarrekin podemos debemos hablar de políticas integrales y no parcelar la visión a una mera cuestión económica o insuficiente

una incoherencia respecto a la postura que defendimos en el mes de marzo como insuficiente consideramos que sería enfocar la solución de la baja natalidad solo con una política

y preferimos invitarles a votarla para que las políticas integrales permitan que la ciudadanía vasca
aborde sus vidas con más y mejores garantías besterik ez mila esker eskerrik asko guanche

a la necesidad de establecer una nueva estrategia de actuación que dé respuesta de una manera contextualizada en tiempo y en forma a las nuevas realidades y problemáticas emergentes

las instituciones deben garantizarla con servicios públicos que lo hagan posible pero lo que hoy se nos trae aquí no es eso es más

que debemos de superar con el fin de buscar políticas que se mantengan en el ámbito

y lo que proponemos los socialistas es que la ley nos garantice a todos ocuparnos de nuestras familias sin que sea penalizada la trayectoria profesional

para eso las instituciones deben impulsar medidas de conciliación en el ámbito del trabajo todos tendremos que atender en nuestra vida

son necesarios servicios sociales que permitan a los familiares proseguir con una vida normalizada sin descuidar a los suyos los socialistas

y en euskadi de los derechos sociales de las pensiones de la sanidad de la educación y no nos cansamos de clamar que debemos construir sin más dilación

de la protección social con un criterio similar no subsidiario no asistencialista sino con servicios sociales que garanticen el derecho en este caso a conciliar la vida laboral y familiar

y mientras esto no ocurra mientras no afiancemos

mientras no tengamos medidas que faciliten la conciliación horaria

serán necesarias las ayudas porque el sistema falla el sistema va a seguir fallando y las ayudas van a seguir siendo necesarias si no nos tomamos en serio esta cuestión

que los padres y madres tengan los hijos e hijas que deseen sin temor a perder su empleo ni su bienestar hoy los esfuerzos deben centrarse más en quienes más han sufrido las políticas de austeridad de los últimos años que quienes están no dejen de formarse o de buscar un nuevo empleo porque deben atender a su hijo o a un mayor dificultando más su inserción laboral que quienes han visto que les bajan atiendan a sus familiares sin que aún se reduzcan más sus ingresos y no puedan pagar una alternativa que las cabezas de familias monoparentales no sigan haciendo malabarismos para ocuparse de sus allegados

a ser padres y madres que cada uno pueda elegir su modelo de familia

un riesgo de exclusión y es que el incremento de la precariedad la inseguridad laboral el elevado

entre otras cuestiones han afectado a la natalidad y a las condiciones de la infancia las ayudas deben de garantizar esa conciliación en esas circunstancias

lo que hay que hacer pensando en el presente pero sobre todo en el futuro de euskadi es culminar la elaboración de una estrategia vasca de inversión en las y en la infancia y es que esta estrategia sería deseable que se pusiera en práctica con el mayor consenso posible porque los réditos de las estrategias se consiguen con el paso de los años y eso exige una estrategia global que no cambie cada poco tiempo sino que se mantenga y perdure para que

que permitan mejorar las tasas de natalidad y que esta estrategia se le dé participación

estrategia que ha de ir unida a un cambio cultural y social

va a ser concluido dentro del primer trimestre de dos mil dieciocho y tendremos antes de finalizar el año el cuarto plan de apoyo a las familias

me imagino que intentaremos

poder terminar hoy este periodo de sesiones de por la mañana y antes de llegar a la votación porque yo creo que la enmienda transaccional que tenemos

avanza bastante en todo este campo y a parte de incluir otras cuestiones que con posterioridad voy a hacer mención

a las patronales a los sindicatos y a las organizaciones del tercer sector el retraso precisamente ha sido derivado porque han pedido precisamente estas patronales sindicatos estas organizaciones

acabar de concluir y culminar precisamente todo lo que es el texto de esta estrategia por eso consideramos importante y porque hemos dado esa importancia al máximo consenso creíamos que era importante también

pero en todo caso ya la propia propuesta que nosotros hemos puesto encima de la mesa plantea que tendría que traerse ya culminada y finalizada

y que debe ser desarrollada y completada entre otros planes

dentro antes de que termine este periodo de sesiones porque con más personas mayores con limitaciones funcionales y con necesidades de favorecer la libertad

es un juego de malabarismo que más allá de cuestiones económicas afecta al propio desarrollo personal y profesional y a la igualdad entre

la apuesta de los socialistas por tanto es avanzar en esta estrategia que se mantenga

que se han demostrado que no funcionan por sí solas no hacer solamente políticas cortoplacistas sino que debemos de andar y avanzar hacia un modelo

de maternidad y paternidad con horarios laborales más flexibles pero a petición del trabajador no por imposición del empresario porque eso consigue el efecto contrario

mejorar las condiciones laborales de los jóvenes para que puedan emprender su proyecto de vida

que tienen en la actualidad nosotros ponemos nuestro objetivo en la universalidad y ese el derecho subjetivo para todos vendrá de la mano de la construcción de ese cuarto pilar del estado de bienestar y un sistema integral de protección social si lo hacemos el debate de estar solamente en las subvenciones pero mientras tanto es bueno seguir mejorando en esas ayudas sociales creo que

transaccional que está propuesta está encima de la mesa aumenta no solamente en lo que yo he señalado sino que ya plantea también un incremento de estas ayudas a lo largo de la legislatura en un cincuenta por ciento además de lo que se ha venido

de años anteriores con lo cual yo creo que se avanza bastante ahí

para llegar a un acuerdo nos está distanciando solamente una palabra en una frase yo creo que tenemos que tener con uno de los grupos por lo menos con el partido popular en estos momentos a lo mejor podemos avanzar pero

y por otro lado también va dirigido para ir eliminando progresivamente desde el ejercicio dos mil ocho hasta el final de la legislatura la reducción del siete por ciento prevista en las leyes de presupuestos en lo relativo a las ayudas económicas por hijos e hijas y de conciliación de la vida familiar y laboral creo que da un paso más y avanza más

a incorporar como principios y ejes intervención el interés superior del menor al que una estrategia de familia siempre tiene que hacer referencia y también hace referencia a la corresponsabilidad

de género dentro de esa estrategia y ese plan que es también bastante importante para avanzar en ese modelo nuevo y por otro lado también y por último hace referencia a reconocer y apoyar la diversidad familiar a fin de establecer el mismo grado de reconocimiento de protección social a todos los niños o niñas con independencia del tipo de familia en que convivan

aportaciones además esta enmienda transaccional que han ido presentándose además por los diferentes grupos no solo por el grupo nacionalista vasco socialistas vascos y el grupo popular

recoge puntos en los que ya venían incluidos dentro de las enmiendas a la totalidad realizadas por el grupo eh bildu y elkarrekin

creo que podríamos hacer un esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo porque la suma de todos los puntos creo que avanza bastante y si no conseguimos llegar a un acuerdo pues lógicamente nuestro

y el grupo nacionalista vasco votaremos nuestra enmienda a la totalidad pero yo creo que sería una pena porque la enmienda transaccional que se ha presentado es bastante amplia y yo creo que avanza en la línea en que todos los grupos queremos que se avance

aterako zen digo que en el mismo sentido que el señor urrutia nos plantea que nos abstengamos en su propuesta

ellos en la propuesta del partido popular y así sale la propuesta del partido popular bueno creo que

a ese párrafo porque creo que en relación al resto de los términos de la iniciativa

con nuestras iniciativas pretendemos un mayor liderazgo de este gobierno en las políticas de familia que hasta ahora no lo hemos visto y a los hechos nos remitimos retraso en la estrategia

próximamente para llegar en el dos mil quince cuando ya había borradores en la anterior legislatura retraso en el plan cuya vigencia ha acabado en el dos mil quince y en el dos mil diecisiete todavía a punto de finalizar no tenemos un plan sí coincidimos

pero para nosotros las ayudas son muy importantes y sobre todo teniendo en cuenta que en el último informe en la evaluación

el ochenta y ocho por ciento de la sociedad vasca considera que estas ayudas son favorables y había que incrementarlas

de estas ayudas por parte de las familias y también en relación a que se pueda incrementar una aceptación

una demanda muy importante en relación a que se incrementen también ha llamado la atención imagino que les habrá llamado a todos ustedes que es una cuestión a reflexionar por parte de este gobierno

el gobierno tiene que emprender acciones específicas para dar la vuelta a esta situación decía que no solo hablamos de ayudas pero sí que tienen que ocupar un lugar muy importante hablamos de mayores inversiones públicas de conciliación de fiscalidad

bueno hoy vamos a conocer los términos pero parece ser que la propuesta fiscal del partido nacionalista vasco y el partido socialista no es beneficiosa para las familias vascas y creo que el poder

fiscalidad más favorable a las familias vascas también podría redundar en dar un impulso a las políticas

las ayudas a las familias recordar también la situación y tanto que nos gusta compararnos en euskadi

pues cómo están las ayudas en otros países hasta los dieciocho años alemania ciento ochenta y cuatro euros mensuales noruega ciento veinticinco y países como dinamarca suecia suiza y austria entre ciento dieciocho y ciento noventa euros mensuales muy lejos de esa convergencia que ya además

y finalizo señora presidenta diciendo que en relación al acuerdo propuesto

se remita antes de finalizar este periodo de sesiones que el plan se remita en el primer trimestre de dos mil dieciocho

a la previsión del acuerdo presupuestario de reducir el siete por ciento progresivamente a partir del ejercicio dos mil dieciocho el recorte que se venía produciendo desde el año dos mil doce en las ayudas a la conciliación y la vida familiar y vamos a ver si finalmente en este punto clave que es donde el gobierno tiene que adquirir un compromiso en relación a las ayudas a las familias

los grupos que apoyan al gobierno porque no quieren el término incrementar obviamente porque habla de un compromiso claro en relación a esta cuestión pues podemos buscar otro término pero tiene que ser un término que desde luego refleje algún tipo de compromiso por parte del gobierno vasco porque si no también este acuerdo

urrutia y señora sánchez que podamos llegar a un acuerdo y lamento que con los otros grupos no se haya podido llegar a un acuerdo por lo menos hasta este momento besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

aprovechamos también el minuto de publicidad para pedir que también se pueden abstener a la propuesta de elkarrekin podemos y eh bildu como no puede ser de otra manera y solo

al igual que el abordaje de las políticas del incremento de la natalidad ha de ser un abordaje integral y ahí es donde está la mamia del desacuerdo de hoy

apostamos por medidas que apuesten por un empleo de calidad por medidas que aborden la desigualdad de acceso al empleo pero también de acceso

y también apostamos por medidas que doten de derechos a todas las vecinas y vecinos que residen en euskadi en este sentido las ayudas y las prestaciones son una herramienta no un fin en sí mismas en ese sentido uno de nuestros límites no lo vamos a negar

y que el señor urrutia ha manifestado necesaria y la señora sánchez también no sea integral para todas aquellas prestaciones económicas a las que afecta porque

aceptar esto de alguna manera es aceptar que con una mano

en una situación en la que no solucionamos el problema de fondo nosotras

que en esta negociación ha habido avances ya en aras a la necesidad de un consenso que no hemos negado y que consideramos que es importante en el mes de marzo la posición de nuestro grupo fue la de abstenernos y en función al acuerdo al que se llegue valoraremos cuál va a ser nuestra posición en este

un portazo sino poniendo nuestras condiciones y nuestros límites para el abordaje de políticas integrales aprobamos positivamente algunas de las cosas que están sobre la mesa porque no se puede pretender

de agentes sociales como no puede ser de otra manera pero seguimos creyendo que hay un planteamiento de partida que genera una desigualdad en el abordaje de esas políticas que ayudan a la conciliación en el abordaje de esas políticas

hijas e hijos que no se está viendo reflejado en este acuerdo como tampoco se vio reflejado en el acuerdo de marzo y por eso simplemente vamos a manifestar

del acuerdo al que lleguen invitarles de nuevo a abstenerse en nuestra

planteamendu berdinak eta desde luego

que seguramente teníamos más puntos que nos unían que que nos alejaban y

hay acuerdos amplios y seguramente cuando la señora artolazabal plantee ese pacto de las familias pues tengamos oportunidad de hablarlas

a puntos en común lo que pasa es que hay un elemento que es central que nos aleja de manera muy clara y es que

a todas y el planteamiento de reducir la disposición adicional y esa reducción solamente

medidas de apoyo a las familias teniendo en cuenta que como ya se ha explicado y ya dice el informe de evaluación son las familias con más dificultades las que no acceden a esas ayudas

dejan a un montón de familias sin poder recibir el apoyo que podían tener de esas medidas y además porque

se entra en contradicciones hacemos esos planteamientos de apoyo a la familia y sin embargo apoyamos

en otras partidas que inciden directa directamente en las situaciones de familias con más necesidad y ese elemento nos aleja

después de los diferentes debates y oídos a los diferentes grupos políticos con representación en la cámara creo que en el

todos creemos que es mejor avanzar y no quedarnos solamente en políticas asistencialistas

que ellas por sí mismas no consiguen un cambio en las tasas de natalidad

de natalidad existente en la actualidad si no van acompañadas de otro tipo de políticas y esas políticas además se tienen que mantener a muy largo plazo

de un día para otro sino que esa estrategia se tiene que mantener de una forma estable y por tanto por eso decía yo en mi primera intervención

que salga lo más consensuada posible porque si sale consensuada todos los distintos grupos parlamentarios organizaciones y asociaciones empresariales sindicales etcétera y organizaciones del tercer sector si también

repercutirá en unos resultados mucho más positivos a lo largo del tiempo que es para lo que se persigue esa estrategia luego esas estrategias se tienen que plasmar en diferentes planes

porque es muy trasversal luego uno de los cuales de estos es el plan de ayudas

esa estrategia que va dirigida a las familias y a la infancia

anterior nosotros la rechazamos porque en ese momento

los presupuestos se había producido un incremento dentro del mismo de las ayudas que coincidía además justo con el debate

fue rechazada yo creo que ahora mismo estamos en un momento diferente tenemos a las puertas la estrategia ya de apoyo a las familias y a las menores

el cuarto plan de ayudas a las familias y yo creo que ahí pues estamos más avanzados que estábamos en ese

anterior y yo creo que la inclusión de todos los puntos que recoge

la enmienda transaccional que nosotros proponíamos es bastante amplia y además se había hecho un esfuerzo dentro de la misma como ya he dicho a recoger diferentes puntos que además en una estrategia son lógicas y que consideramos que era bueno

y a la diversidad familiar creo que son puntos importantes que tiene que tener en cuenta que va a tener en cuenta esa estrategia

que recogerse dentro de esta enmienda transaccional creo que eran positivos para plasmar precisamente cual es la filosofía de fondo precisamente y por donde tiene que ir

el modelo europeo y en otros países en europa y yo creo que en nuestra propuesta es bastante completa y que avanza en un incremento importante también aunque sea a corto plazo de momento pues eso al menos servirá mientras no vayamos avanzando en la estrategia y en los planes bueno por lo menos a corto plazo sirve

dar unas ayudas a las familias para fomentar esa conciliación y nuestra propuesta supone un incremento del cincuenta por ciento de las mismas respecto

respecto a lo que tenemos ahora mismo y eso es bastante importante y aparte la eliminación de la reducción del siete por ciento pero

laboral que es lo que hoy nos ocupa la materia que hoy nos ocupa y por tanto yo creo y espero que podamos llegar

la mañana hoy tenemos esa oportunidad ya que votamos al final de la mañana y

bueno espero que eso sea así porque yo creo que será positivo y además recoge muy bien por dónde tenemos en el futuro y que avancemos ya aunque se ha retrasado un poco esa estrategia porque lo han pedido las propias asociaciones para conseguir un mayor

que avancemos y que lo pongamos en marcha sin mayores retrasos porque creo que es muy necesario para conseguir esos cambios necesarios en esta política

los resultados se ven a lo largo del tiempo nada más y muchas gracias eskerrik asko sanchez andrea euzko abertzaleak urrutia jauna

gauza komentatzeko erabili nahi nuke decía la señora garrido que no está el lehendakari ni está la consejera y es que si nos cambian el punto de hora las agendas se suelen complicar

que este gobierno no tiene no tiene como preferencia

no voy a empezar a detallar creo que en la propia interpelación la señora consejera

la contestó debidamente hablaba usted de un considerable retraso

tiene que ser el inicio de un nuevo camino

que comienza a desarrollar esa estrategia de la que estamos hablando y de la que nos gustaría desde luego que estuviera cuanto antes y tal y como se dice en nuestra propuesta de transacción antes de la finalización del actual periodo de sesiones me pasa una cosa muy curiosa

mire leo la iniciativa parlamentaria de la señora garrido y leo las enmiendas tanto de usted como de la señora kortajarena y creo que estoy más cerca de la señora garrido

a nivel de discurso en tribuna y oigo a la señora kortajarena y pienso

la diferencia es mínima lo que pasa es que yo destacaría ahí la diferencia en la visión de la voluntad de acuerdo

no puede ser establecer una línea roja de la que yo no me muevo y después critico de que el de enfrente no se ha movido lo suficiente

cuando en realidad el acuerdo sería perfectamente posible incluso hoy

yo no sé si usted comparte el discurso que he hecho yo en el primer turno yo

pero resulta que el acuerdo no es posible beno geldituko naiz

del siglo veinte y decía que había dos maneras

retardar lo inevitable y tengo la impresión de que aquí nos ha pasado algo de eso a todos probablemente a todos pero nos ha pasado algo de eso no sé si a lo largo de la mañana tendremos ocasión de corregirlo pero

pues la verdad creo que no pero bueno seguiremos seguiremos

seguiremos tratando de llegar a acuerdos nosotros por nuestra parte no quedará porque además es que en la propuesta de transacción que se propone se incluyen

muchos de los puntos y sigo pensando el problema está en la rgi se quieren agarrar a todos esas ayudas

tiene su estrategia y yo la respeto pero espero

que a partir de la presentación de la estrategia podremos abordar los temas de otra manera y podremos

desde una perspectiva más amplia porque en esto creo yo que las ortodoxias ideológicas no proceden

esto es una cuestión en la que nos estamos jugando todos nuestro futuro y al igual que otros temas como por ejemplo las pensiones la educación
o el euskera nos necesita a todos eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

hoy ponemos sobre la mesa una vez más la cuestión de la seguridad social la cuestión de una transferencia de una competencia que está pendiente desde hace ya treinta y ocho años una transferencia que todos los sucesivos gobiernos de madrid

una transferencia sobre la que insistentemente representantes del partido popular y del partido socialista obrero español

utilizando para ello el espantajo del miedo sin ningún pudor y ese halo paternalista sobre el autogobierno

una competencia sobre la que los aparatos del estado con el tribunal constitucional a la cabeza no han dudado en incidir limitándola y ampliando la competencia

incluso a sustituir al legislador yendo más allá de lo que dice literal incluso de la propia constitución española

que alardean del cumplimiento de la ley aquellos que hoy ondean la bandera del estatuto aunque sea solo una vez al año son los que sistemáticamente vienen incumpliendo

es por todos de sobra conocido que desde euskal herria bildu aspiramos a un sistema de seguridad social propio y completo y sé que más de uno saldrá hoy

hoy está sobre la mesa lo que hoy euskal herria bildu pone sobre la mesa es algo muy distinto se trata de volver a reclamar lo que nos corresponde se trata

las bases firmes y la orientación de una transferencia importante la del régimen económico de la seguridad social que hace años hace ya demasiados años que tenía que estar en nuestras manos una transferencia

ese sistema propio en beneficio de la sociedad vasca un sistema propio público que debe garantizar unas prestaciones económicas

sobre todo a las personas mayores y esto es algo que el sistema español en día no garantiza por ello por esa necesidad de dar pasos en la dirección adecuada pedimos a este parlamento que se reafirme en la decisión tomada

en aquel momento los dos grupos principales de esta cámara hicimos una lectura común y llegamos a un acuerdo de calado que consideramos que tiene que ser

que señale el camino a realizar eta hori da gure gaurko proposamena

hori guztia hain ona omen den estatuko sistemaren pean la seguridad social española se encuentra en una encrucijada

de crecer a pesar de las reformas llevadas a cabo los últimos años que la verdad

ha sido en todo momento reducir el gasto y los ingresos por cotizaciones no acaban de despegar aun reduciéndose el nivel de desempleo porque cada vez los salarios son más bajos la temporalidad de los empleos es mayor y las bonificaciones a las cotizaciones sociales están ahí presentes todo ello efecto directo

emprendidas y realizadas desde los gobiernos de madrid de hecho ya en el año dos mil quince los gastos por prestaciones aumentaron casi tres veces más rápido

la nómina mensual de las pensiones ha aumentado un sesenta coma siete por ciento mientras que los ingresos por cotizaciones se han mantenido prácticamente estancados y a este sistema

al que estamos atados atados de pies y manos estatuak bere osotasunean kontrolatzen du indarrean dagoen pentsio sistema

eztabaidara nuestra propuesta de hoy es de sobra conocida por todos y todas una propuesta que contiene el acuerdo alcanzado en este mismo pleno en marzo

hoy esperamos sinceramente que recabe como mínimo los mismos apoyos porque hoy seguimos sin tener las competencias sobre la seguridad social en las instituciones vascas porque hoy las lecturas estrechas cicateras y recentralizadoras que la legislación española y el tribunal constitucional

siguen ahí presentes inamovibles porque hoy

ejecute y gestione por y desde las instituciones vascas para el mantenimiento de un sistema de protección social público digno

con lo que tenemos y que por lo tanto para qué meternos en transferencias pendientes hoy

porque ya es hora porque no se puede seguir esperando porque una cuestión tan fundamental para el bienestar de la ciudadanía vasca

del intercambio de favores en definitiva del mercadeo puro y duro es nuestro derecho y es nuestro deber hoy aquí

hace ya demasiado tiempo porque la ciudadanía vasca lo merece porque visto lo visto hay margen para hacerlo mejor mucho mejor

en esta ocasión eh bildu básicamente lo que pide es la reafirmación de un acuerdo al que ya llegaron en la anterior legislatura en marzo de dos mil dieciséis el partido nacionalista vasco y el grupo proponente eh bildu

para reafirmar para que este parlamento reafirmase en algo que ya habían aprobado hace escaso año y medio a nosotros

que si vamos a debatir sobre lo mismo sobre algo que ya ha dicho este parlamento y que la correlación de fuerzas

que al parecer han entrado pues el debate debería avanzar y no deberíamos quedarnos solo

algo que ya había dicho y por eso nosotros hacemos una enmienda que no hablase solo de las transferencias y porque además como siempre nos parece que junto al debate de transferencias sí transferencias no transferencias ahora transferencias más tarde tiene que ir el debate de cómo hacemos esas transferencias para qué las hacemos y sobre qué modelos queremos basar las cuestiones

transferir y por lo tanto nosotros hacíamos una enmienda que no hablaba solo de transferencias por supuesto estamos de acuerdo en que ya es hora hace mucho tiempo que era hora de nada más y nada menos que cumplir el estatuto de autonomía que se firmó hace muchos años pero pensamos que de una cuestión tan importante de la que estamos hablando

qué modelo queremos si se va a transferir tenemos que decirle a la gente qué modelo queremos y creemos que aquí

entre los diferentes grupos y creo que tenemos serias diferencias con uno de los grupos que firmó en marzo de dos mil dieciséis con ustedes esta iniciativa y por lo tanto nos parece peligroso quedarnos

solo de las transferencias la iniciativa viene otra vez a hablar básicamente

y nosotros no le restamos importancia al dónde se hagan las políticas pero lo importante nos parece que esto tenga que ir acompañado de cómo se hacen esas políticas de qué políticas queremos hacer

entre los grupos el partido nacionalista vasco y el partido socialista plantean una enmienda y también nos lo hicieron saber para intentar llegar a un acuerdo

habla y en este sentido creo que no es diferente a la del grupo proponente en este sentido en el de que solo hablamos una vez más de la transferencia y no entramos

el modelo de la seguridad social y el modelo de las pensiones que es efectivamente yo comparto absolutamente importantísimo y por lo tanto a nosotros

que incluso viendo la posibilidad de acuerdos de mínimos en muchos temas en este caso no era positivo porque es algo que ya tiene la sociedad claro que queremos la transferencia de la gestión de la seguridad social la mayoría de esta cámara más allá de cómo cada uno luego interpretemos

es que pongamos sobre la mesa qué modelo de pensiones queremos o qué modelo de sistema de pensiones queremos y por nosotros por lo tanto planteamos qué tipo de sistema queremos y tenemos muy claro que queremos un sistema de reparto porque esto es un debate ideológico profundo que no se da solo en euskadi que no se da solo en españa un debate ideológico entre dos

uno basado en sistemas de reparto públicos como el que tenemos actualmente mejorable y que en estos momentos está siendo atacado desde hace muchos años o modelos basados

en mayor o menor proporción y creemos que ahí está una de las diferencias que tenemos por supuesto con el partido popular pero también con el partido nacionalista vasco

en sus documentos ellos defienden un modelo donde las pensiones privadas tengan un mayor peso y en nuestra opinión eso significa adelgazar

están ahí no vamos a decir que se prohíban pero creemos en un sistema que sea capaz de garantizar la suficiencia de las pensiones desde lo público y acercar a los ratios de reposición respecto a los salarios desde lo público que acercarnos a los ratios de reposición no tenga que depender sistemas de protección privados complementarios entre otras cosas porque esos sistemas está demostrado que solo pueden acceder a ellos las rentas

quedan desprotegidas las rentas más bajas creemos que el actual sistema es viable

es un sistema de los trabajadores y para los trabajadores no es un sistema de españa es un sistema de los trabajadores

entre generaciones y entre territorios y es un sistema que si se realiza en base a esos principios es un sistema

es que se está intentando desmontar precisamente este sistema

y para llevar a las decisiones políticas a decir como siempre también como en el debate que tuvimos la semana pasada que no hay dinero para mantener el sistema y que por lo tanto

eso no es verdad y nosotros proponemos por eso nuestra enmienda

hasta ahora las últimas reformas que se han hecho inciden solamente en los gastos del sistema por supuesto cargando en la espalda de los trabajadores los recortes y nadie habla de ingresos

entre otras cosas porque a cargo del fondo del sistema de pensiones se pagan cosas que no se deberían de pagar por ejemplo reducciones de cuotas para la creación y financiación de contratos de trabajo que deberían salir

o por ejemplo el pago de la gestión del propio sistema que debería salir también de las arcas públicas son los únicos funcionarios que no cobran

que debiera ser de las y los trabajadores nosotros pensamos por lo tanto que no se puede reducir este debate una vez más

y nosotros estamos dispuestos a hablar del dónde en base al cómo porque a nosotros no nos vale con decirnos que el simple hecho de tener un sistema

y va a ser mejor para los trabajadores que es lo que nos interesa no nos vale igual que tampoco nos vale con decirnos que de por sí el sistema actual es mejor que cualquier otro que pudiesemos crear no nos vale nos vale en función de qué tipo de sistema tengamos lo que si tenemos claro es que los sistemas de reparto y de solidaridad

se ha demostrado también que son más eficientes eso se ha demostrado en toda europa y por lo tanto a nosotros sí que nos parece peligroso plantear nuevos modelos si no sabemos exactamente cómo van a ser y hoy aquí nadie nos ha planteado cómo quiere que sea

por lo tanto nosotros no hemos podido llegar a acuerdos con ningún grupo y mantenemos nuestra enmienda donde hablamos de qué tipo de modelo de pensiones queremos queremos un modelo de pensiones que garantice

de estas y que por lo tanto no haya que recurrir en ningún caso a pensiones privadas y denunciamos las políticas que se han hecho efectivamente adrede para recortar e intentar hundir este modelo que todavía no está hundido y nos resulta especialmente

la enmienda del partido popular donde sí habla de transferencia pero además habla de un modelo basado en el concierto social

cuando ustedes se han cargado toda posibilidad de acuerdo respecto a esta materia

no creen en ese acuerdo social ni creen en este sistema de pensiones no creen en él han ido a marchas forzadas y cuando han tenido mayorías absolutas lo han recortado

y los trabajadores han reformado la ley a su antojo de manera unilateral para meterle

y al fondo de reserva reformaron la ley de manera unilateral y por lo tanto ahora nos parece absolutamente hipócrita que lleguen a este parlamento

donde llaman al pacto de toledo y al pacto social hace falta cambiar el modelo de pensiones que tenemos sí porque lo han atacado en los últimos años con objetivos ideológicos concretos nosotros en eso estamos de acuerdo pero el simple hecho de las transferencias no nos va a poder permitir hacer eso

hacia qué modelos queremos caminar cada uno de nosotros y nosotros creemos que no estamos de acuerdo con el modelo del partido nacionalista vasco creemos que ellos ponen peso en

complementarias y eso en nuestra opinión reduciría un sistema público que garantice a todos los trabajadores y sobre todo a los que menos han ganado durante su vida laboral unas pensiones

muchas gracias señora presidenta quizás voy a empezar por el final y por el representante de elkarrekin podemos

mire usted se inventa un debate ideológico donde no existe entre un sistema público y uno privado que nadie propone ni ha propuesto hasta donde yo sepa

se han reducido los beneficios fiscales para las aportaciones particulares a los fondos por lo tanto en dirección contraria al debate que supuestamente usted

y usted dice que el sistema actual es bueno verdad y es viable claro y yo fíjese coincidimos

y para eso hay que crear empleo cosa que a usted se le olvida

y luego es que yo no sé por qué confunde usted y dice los trabajadores de la seguridad social cobran del fondo de pero que está diciendo cobran del inss

el fondo que le voy a recordar lo creó el partido popular cuando gobernaba lo creó el partido popular cuando gobernaba porque cuando llego en el año mil novecientos noventa y seis estaba quebrada usted que dice que el partido popular no

dos veces dos veces

a pedir prestamos a la banca internacional para poder pagar y por eso se creó el fondo

para que cuando haya una crisis económica y hay menos ingresos se pueda tirar de esos ahorros

y los pensionistas cobran del inss el fondo es una hucha

y no era el pp ni un gobierno del partido popular entonces oiga

dos veces llevamos salvando el sistema es más parece que los españoles nos votan para que salvemos el sistema de cuando gobierna la izquierda

y a bildu le tengo que decir que nos trae una proposición que nos parece muy bien nosotros trajimos este debate hace año y medio y a mí me extraña y me sorprende que digan cómo es tan cínico el partido popular que dice que se cumpla el estatuto y la constitución es que oiga nosotros pedimos que se cumplan las leyes siempre

siempre lo que pasa es que hay algunos que tergiversan las leyes para decir que no se cumplen especialmente el estatuto de autonomía

porque el nacionalismo necesita la matraca para seguir con la matraca

hombre a mí me sorprende un poco la postura del partido socialista yo les voy a leer lo que ustedes decían hace exactamente año y medio su representante que firmo con nosotros la misma enmienda que traigo yo hoy

por mucho que se empeñe el pnv en esta materia no existe un incumplimiento del estatuto por parte de la administración central esto decía el partido socialista

decía pero su empecinamiento en esta interpretación que ya retrasó durante muchos años la transferencia de las políticas activas de empleo y también es verdad porque al final que cuando un gobierno no quiere recibir las transferencias pues nos las recibe y hace la interpretación que quiere

la diferencia es que hoy está con ustedes en el gobierno hoy no sé lo que nos va a decir hoy no sé lo que nos va a decir pero yo sí

y nos hablarán del déficit es que hay que tener valor

de que si gestionáramos nosotros desde el país vasco las pensiones mejor nos iría fenomenal entonces yo le pregunto a usted oiga y un déficit anual de más de tres mil millónes déficit pero qué gestión mejor va a hacer

si tuviera superávit y no tenemos un ahorro de mil vamos a ver cómo lo gestionamos mejor y

al año qué gestión mejor hombre se me ocurren varias

para que cuadre esa la hicieron en grecia el referente que ustedes nos trajeron la legislatura pasada a hablar de este tema

y a los tres meses estaba recortando las pensiones en grecia el treinta por ciento claro ese es el otro modelo ese no es nuestro modelo pero ese modelo ya lo hemos visto hemos visto cómo funciona pero cómo no le voy a hablar de déficit pues claro que le tengo que hablar de déficit

y si usted se fija en las previsiones del gobierno vasco los datos del eustat es que este debate lo tuvimos hace año y medio

son todos peores son todos peores

que cuando se crea el fondo y el sistema funciona muy bien en el resto de españa los vascos no aportábamos

oiga sin paro sin paro hace más de diez años que somos deficitarios pero sepa usted que los pensionistas lo saben eh claro claro no es que los pensionistas lo saben

a mí todos los modelos me parecen fantásticos lo que nadie nos dice es en todos estos nuevos modelos cómo se paga y quién paga claro cómo se paga

hoy ya serán tres mil trescientos ya veremos cómo acaba el año que viene

porque esto va así llevamos así diez años así llevamos diez años

porque como cada vez hay más gente jubilada y menos activos pues hay menos paro y al gobierno le sale fantástico y nos propone que dentro de al acabar esta legislatura estemos en el menos del diez por ciento de paro pero si sale solo según nos vamos jubilando los vascos y de esos puestos que se jubilan la mitad

al final quién aporta pues nada seguimos siendo como decía hace treinta y cinco años dos millónes cien mil o dos millónes doscientos mil seguimos siendo

treinta y cinco años más mayores y este es el sistema vasco que nos están proponiendo ustedes

y yo aquí tengo que plantear una cosa porque claro el debate este lo importante el planteamiento del gobierno vasco porque aquí no nos vamos a engañar los que gobiernan son estos señores con aquellos señores

porque si leo la ficha la treinta y cinco que han planteado ustedes en las nuevas transferencias

tiene gracia porque cuando la señora pinedo nos habla del tribunal constitucional oiga el tribunal constitucional resolvió esto ochenta y nueve a instancias del gobierno vasco del pnv fíjese usted que nadie esperaba que en españa gobernara el pp en siglos

quién planteó ese recurso que se les estimó en parte se les estimó en parte claro y en una democracia en una democracia

cuando dos partes tienen interpretaciones distintas acuden a los tribunales para que los tribunales digan cuál es la correcta

y desde entonces el pnv le llama mercancía averiada mercancía averiada a esa transferencia y cuando usted pide la transferencia qué está pidiendo la mercancía averiada no o sea la que deben en estatuto y en la constitución y como tiene interpretado esa usted no la quiere

entonces dejen de mentir señores nacionalistas de un signo y de otro y reconozcan que no estamos hablando de una transferencia del estatuto ni de la constitución sino que estamos hablando de una reivindicación que ustedes quieren un modelo de gestión propia porque van a gestionar fantásticamente

y de nuevo esta cámara tiene que debatir sobre la transferencia del régimen económico de la seguridad social esta vez de la mano de una propuesta de eh bildu pero hace año y medio esto lo debatimos a instancia del partido popular curioso verdad los extremos

de modo que aquí vamos a estar de nuevo yo no creo que le sorprenda señor antón damborenea con lo que voy a decir no porque entre aquella propuesta del partido popular que quiso y quiere presentarse que es curioso como paladín del sistema público común después del tajazo que le metieron a las pensiones tras la espoliación

que aprobaron usted en solitario y sin importarles lo que decía el pacto de toledo y que fue una autentica contrarreforma ideología del sistema de las pensiones y tras haber dilapidado porque ya hoy hace igual un año todavía podía decir aquello de si se iba a acabar o no el fondo de pensiones se agota

algunos dicen que usted comentaba que alguno quiso jugar en bolsa que no lo hizo

ese es igual el problema que tiene el sistema de pensiones estatal y luego tenemos la propuesta de eh bildu

aquí uno propio uno particular uno nuestro con txalaparta incluida

el colchón de seguridad que las sociedades avanzadas han creado para asegurar a los ciudadanos unos recursos suficientes al finalizar su vida laboral pero

y los socialistas lo vamos a reiterar con dos cuestiones que nos parece fundamentales y de principio primero

universal solidario que garantice la dignidad de las personas al final de su vida laboral y en esto

de el qué sistema sino de la transferencia de la gestión de ese sistema que nosotros defendemos y defenderemos

en el ámbito en el que nos toca y somos conscientes

está sometida a presiones de distintos signo los efectos de la crisis económica

el problema demográfico gastos e ingresos

no dejar pasar el tiempo como están haciendo otros con un objetivo claro el de mantener el sistema no el de cargarse el sistema y mediante un acuerdo con los agentes sociales y los partidos políticos no de forma unilateral

es el motivo por el que volvemos a instar por un lado al gobierno central a que no demore más tiempo la culminación del proceso de transferencias pendientes

sea prioritaria en la agenda y que esta reclamación y negociación se realice en los únicos términos en que es posible que son los términos que están en la disposición adicional quinta del estatuto de gernika que establece que la transferencia se realizará mediante oportunos convenios

y con minúscula y garantizando el carácter unitario de este régimen económico y el principio de solidaridad y no discriminación del sistema con el resto de la población del estado

es cierto que tampoco han faltado voces en el nacionalismo que ante estos debates insisten en lo esencial de la seguridad social propia y similares pero son sus reivindicaciones de siempre una interpretación propia de lo que no está escrito en ningún sitio y esta versión parcial ha sido

pero lo que ocurre desde el pasado mes de noviembre es que existe un compromiso de gobierno entre el partido socialista y el partido nacionalista y está firmado y dice literalmente a este respecto y de conformidad con el artículo dieciocho punto dos y la disposición transitoria quinta del estatuto de gernika

en el seno de la comisión mixta de transferencias de los correspondientes convenios que regulen la citada transferencia desde el respeto al principio de solidaridad y al carácter unitario del sistema punto eso es lo que está acordado y esto es lo que llevará a cabo

con la colaboración de los socialistas incluimos esta previsión tasada en aquel acuerdo pero no solo eso además le pedimos al lehendakari que creara una carpeta específica de la que los socialistas nos haríamos cargo para preparar esta transferencia y la de prisiones de la que volveremos también a hablar

prioridades que también fueron ratificadas por la consejera de trabajo y justicia en la presentación de las líneas estratégicas del departamento

queremos gestionar la seguridad social pero la queremos gestionar para ser corresponsables de un sistema de pensiones público sin romper el sistema unitario

y para reforzar los recursos contra el fraude laboral y porque tenemos claro cómo queremos utilizar estas competencias para mejorar en la prestación del servicio y reforzar de forma significativa la inspección que es una de la vías para acabar con la precarización laboral esto es lo que hay

porque los socialistas les guste o no somos la garantía de que no permitiremos ninguna de las tentativas de eliminar el carácter público solidario y unitario del sistema de pensiones

porque somos quienes lo construimos este sistema público y solidario porque fuimos quienes garantizamos que quienes no habían podido contribuir lo suficiente también tuvieran unos ingresos mínimos

en plena crisis industrial en plena reconversión y en plena modernización del país

que cada vez habrá más jubilados que cobraran merecidamente su pensión y durante más tiempo y eso es una buena noticia eso no es un riesgo

acceden a empleos precarios ganan poco y cotizan poco y esto junto a otros factores que tiene que ver con esa nefasta cesión que el partido popular está haciendo en esta materia

a la seguridad social con las políticas de empleo y trasladando directamente dinero de reducciones y bonificaciones de la seguridad social directamente a los empresarios en vez de proteger el sistema en vez de adoptar reformas por unas cálculos electorales de quienes sociológicamente

ustedes han estado metiendo mano y retrasando las reformas pero está claro que esto

y sabemos que hay dificultades como ya le he comentado y habrá que buscar soluciones y habrá que ponerse en ello con un objetivo claro para nosotros muy claro mantenimiento de un sistema público de pensiones y eso es en lo que debería señor antón damborenea estar volcándose quienes en este momento

y que están ustedes demorando como muy bien le he dicho por intereses espurios de cálculos electorales

ni perjudiciales para el conjunto de la sociedad vasca ni para los pensionistas de hoy y de mañana

no solo por fidelidad con lo que se acordó en mil novecientos setenta y nueve sino también porque creemos que esa fórmula

es la más conveniente para todos los pensionistas vascos de hoy y de mañana y vamos a defender y defenderemos que este sistema tiene que ser público solidario y

me van a permitir brevemente que empiece por algo que me ha resultado llamativo de esta iniciativa

que debatimos en este pleno de eh bildu es una iniciativa para que el gobierno vasco negocie con el gobierno de españa si fuera periodista titularía le daría ese título sí eh bildu insta a a negociar con rajoy porque en plena ofensiva contra el partido nacionalista vasco contra el gobierno vasco contra el lehendakari urkullu reclamando en distintos ámbitos se rompan todas las relaciones que pueda haber con gobiernos del partido popular o con el partido popular resulta que la primera iniciativa que

vamos a volver a reclamar lo que

hor sartzen da en absoluto lo que nosotros acordamos está reñido

con la interpretación que se hace en el informe de actualización bat nator

eta señor damborenea tengo que decirle que usted una y mil veces vuelve a insistir sobre la

aquí sería menos viable el sistema es deficitario es deficitario en los últimos años en los años de crisis así es pero

euskadi ha sido contribuyente neto y eso en el debate anterior

desde que se creó el sistema en mil novecientos cincuenta y dos creo recordar es decir más de cincuenta años más de cincuenta años siendo contribuyente neto entiendo

saldo más alegre nos corresponderá a nosotros

se realicen a hablar al respecto pero precisamente ese fondo se constituye para que luego se puedan compensar ese déficit usted decía que hay algunos que tergiversan la ley para así de esa forma bueno pues hacer uso del victimismo político

madrid no quiere cumplir el marco jurídico que hemos acordado y de esa forma

que nos dé pie al desbordamiento probablemente del marco jurídico aprobado

cómo es posible que los años que no gobernábamos nosotros que gobernaba el partido socialista con su apoyo no se hizo la transferencia

no se ha cumplido estando los nacionalistas en el gobierno y cuando han estado partidos no nacionalistas en el gobierno vasco tampoco se ha cumplido porque es madrid quien nos niega esa posibilidad incumplimiento de la ley independientemente de quien esté aquí el tribunal constitucional se lo

hace una lectura absolutamente restringida pretendiendo cercenar lo establecido en una ley orgánica por leyes ordinarias

zugaz solo decirle que efectivamente usted se refería nosotros presentamos una enmienda de totalidad con la pretensión de que pudiéramos llegar a un acuerdo lo más amplio posible una enmienda de mínimos donde

espectro para que de esa forma pudiéramos sentirnos más fuertes y el gobierno vasco en esas negociaciones que tendrá que desarrollar con el gobierno de españa pudiera ir más fuerte y es cierto que se ha debatido en reiteradas ocasiones en esta cámara la cuestión lo que también es cierto es que ustedes jamás han votado a favor de nada porque los debates los hemos hecho el resto de grupos parlamentarios pero no ustedes lo que yo no sé es si de alguna forma tímidamente lo que hacen es alejarse de esa

o de un pronunciamiento expreso que pida la transferencia de esta competencia habiendo escuchado su discurso usted decía

señor hernández que lo importante no es dónde se hacen

sino cómo se hacen las políticas y para nosotros para el partido nacionalista vasco como comprenderá es muy importante también

además del cómo que nosotros desde luego nuestro modelo y las propuestas que hacemos las tenemos escritas aprobadas tanto las del partido

de la competencia la tiene usted clara en la ficha que nos han remitido

de modelo si el modelo que se establece es un modelo de solidaridad intergeneracional nosotros no vamos a plantear un cambio de modelo

la queremos tener nosotros usted hablaba de complementos privados

en desacuerdo con lo que el partido nacionalista pretendía en este sentido y lo que nosotros tenemos claro es que los complementos privados que son

apoyamos son complementarios y así los defendemos en nuestro modelo y me gustaría leerle si me permite una intervención realizó el viceconsejero de economía hacienda y presupuestos recientemente hace una semana en unas jornadas que organizó la federación de entidades de previsión social voluntaria y allí

decía no debemos olvidar que la previsión complementaria es complementaria y no se puede disociar del régimen económico público que es fundamental sabemos que los problemas que entrañan la transición demográfica pero debemos esforzarnos lo que es una columna vertebral del estado de bienestar es más creo que un gran paso que podemos dar desde el ámbito institucional para salir del bloqueo

entre otras razones porque las sinergias de esa gestión con la del resto de la protección social son enormes le animo a que apoye nuestra enmienda de totalidad porque va en esta línea

un buen ataque y eso es lo que usted ha hecho hoy pero la propuesta de eh bildu primer punto el parlamento vasco denuncia la no materialización de la transferencia de la gestión del régimen económico

el parlamento vasco insta al gobierno de españa a que dé cumplimiento inmediato a las previsiones recogidas en el estatuto

a que promueva las iniciativas necesarias para la ordenada solicitud eso es lo que ha escrito no

pone que el gobierno vasco no no a esto es lo que pone

que hoy usted ha venido aquí a echar marcha atrás lo que su partido había firmado hace año y medio porque usted me viene aquí y me dice es que ha habido una modificación ha pasado algo en año y medio ha pasado que ha venido un informe de la actualización de las competencias pendientes hombre señora gorospe lo que ha pasado es que usted tiene un acuerdo de gobierno con el partido socialista y el partido socialista en esta materia

eso es lo que ha pasado que el partido socialista les ha dicho que eso de decir que el tribunal constitucional

pues que no y usted ha dicho hoy aquí en el estado del tribunal constitucional ha hecho una lectura restrictiva en relación a la competencia y ha dejado casi pues bueno vamos a decir un poco descongelada la situación pero por qué no lo escribe usted

escrito ustedes que hablamos de la seguridad social y la competencia económica y me dicen

porque ha supuesto un instrumento de vertebración de la consciencia democrática de euskadi de dónde vienes manzanas traigo

se pone a decir lo maravilloso que es el mundo de color de rosa y es que ustedes lo que dicen es que se reserve el lugar prioritario que son treinta y ocho años que son

el primer partido que se negó sistemáticamente a tratar este tema que no vamos a hacer protohistoria que yo tengo la edad que tengo pero también sé leer

y usted también lo sabe o no lo sabe sí lo sabe perfectamente señora gorospe el partido socialista se negó sistemáticamente a hacer la transferencia de la seguridad social es más ustedes gobernaron

no hiciera esa transferencia de la seguridad social y usted lo sabe tan bien como yo porque está en los libros de historia señora

yo entiendo su situación pero ustedes pactaron lo que ha dicho el señor damborenea una transaccional que dice exactamente lo que hoy el señor damborenea

ortográfico señor damborenea negro sobre blanco y yo voy a un sistema de txalaparta

de la seguridad social y evidentemente yo abogo por un sistema propio vasco del sistema de la seguridad social y lo digo aquí y en katmandú porque evidentemente yo soy independentista

lo que hoy he traído aquí es que digamos realmente qué es lo que ha venido pasando sistemáticamente durante treinta y ocho años

que los gobiernos de madrid han hecho modificaciones legislativas para que esta transferencia se quede desgravada y que el tribunal constitucional ha hecho las sentencias que ha hecho

ni está en el estatuto de autonomía y la caja única cuando existía eran en otras épocas y en otras leyes

o sea que por lo menos vamos a hablar un poquito con propiedad visión parcial de la competencia bueno y que ustedes son la garantía me dice de que no se rompa de que el sistema claro claro ustedes son la garantía de que en esta comunidad autónoma no tengamos realmente la competencia de la seguridad social como dios manda

como vino como ha venido alguna otra cosa recortada deslavada y troceada que en eso ustedes son especialistas en trocear y cómo decía aquel en eso el partido socialista es especialista pero para poquito más señora castelo para poquito más y seños damborenea usted y yo en esto pues lo de siempre el déficit me dirá usted misa en latín pero el déficit es del sistema español y usted lo sabe

todas y cada una de las comunidades autónomas del sistema español presentan déficit todas y cada una sí señor damborenea sí señor damborenea así está pasando y además que es que ustedes mismo caen en su propia trampa no me están diciendo que la caja es única y no se rompe qué miedo tiene usted de que gestionemos de aquí qué problema de déficit vamos a tener si según usted

que me gusta porque si usted asume que yo voy a tener el sistema de seguridad social propio y vasco perfecto pero es que no vamos a tener ese déficit por una cuestión muy sencilla porque nuestro sistema va a ser distinto del suyo

en relación a la legislación laboral porque nuestro sistema no va a estar basado en todas esas cuestiones que ustedes se han encargado de meter en la seguridad social por la puerta de atrás

porque lo que está en crisis es el sistema que ustedes se han encargado durante años de dilapidar y de bloquear ese es el problema pero hoy aquí hablamos de la transferencia

van a ir tres pasos atrás porque tienen nuevos compañeros de viaje y luego nos dirán que ellos defienden la transferencia de la seguridad social

un montón de cosas en este texto que usted hoy señora gorospe

en este tema está trincada por el partido socialista eskerrik asko pinedo andrea

en algo que nosotros como ya decía no es que quisiéramos evitar es que nos parece absolutamente incompleto hablar solo sobre las transferencias

no de hace pocos años desde hace muchos años y antes de la crisis y es verdad que quizás antes hubo superávit pero llevamos ya creo que doce años con déficit por lo tanto ya no es un problema coyuntural

pero creo que el problema no es ver si en euskadi hay más déficit o menos déficit que en el conjunto el sistema

tapa el debate de

el sistema en este momento tiene problemas o tiene déficit en su conjunto y de qué medidas se adoptan para atacar a ese déficit porque además detrás de las medidas que se han venido tomando para atacar ese déficit hay una propuesta ideológica concreta que el señor damborenea la negará lógicamente

porque el partido popular yo le reconoceré que claro son inteligentes

determinadas cosas que luego hacen en la práctica porque saben que eso la gente no lo quiere y eso pues se llama populismo y ustedes son

no lo digo lo hago y efectivamente ustedes no le van a decir a la gente que van a tomar medidas

al enflaquecimiento del sistema y que van a llevar a quien se lo pueda permitir a optar por otros modelos y por modelos de pensiones privados

no pretendemos alejarnos de estar de acuerdo con la transferencia de la gestión es verdad que nuestra coalición es nueva

no sé exactamente todos los debates que han tenido pero estoy seguro que compañeros míos de izquierda unida si ha habido este debate habrán votado por esta cuestión en este parlamento también por lo tanto no es nuevo y además en nuestra propuesta que vamos a votar no vamos a votar nuestra enmienda espero vamos a votar también esto

también está solicitar la transferencia y decir que ya vamos muy tarde y además décimos una cosa más que no tiene que ser producto de negociación

por lo tanto nosotros ni eludimos ese debate ni pretendemos

escaparnos de él en absoluto pero creemos que en nuestra enmienda

no basta con estar mareándoles con las transferencias sí o las transferencias no cuando además todo el mundo luego dice

y tenemos diferencias en otras cuestiones por eso pues a mí en cierto modo me disgusta que la señora castelo me diga que no veníamos a hablar de qué modelo sino de las transferencia y lógicamente usted y yo lo entiendo y me parece bien

y efectivamente ha constatado de que en algunas cosas estamos de acuerdo en cuanto a un modelo público universal etcétera bien

sino que si tiene que salir algo de esta cámara que sea indicando esa serie de cuestiones

y por lo tanto no nos vale con un acuerdo de mínimos para una cosa donde ya está claro

hay que ir más adelante y por eso tampoco no nos valía la propuesta que traía eh bildu sin llegar al debate sobre el modelo que ellos llaman propio sin llegar a ese debate

sobre qué tipo de modelo queremos cuando se llega a ese debate porque es verdad que la señora pinedo ha dicho que no era eso lo que proponían hoy en concreto por eso yo no llego a ese debate

es que un modelo afecte solo a nuestro país a nuestra nación o afecte al conjunto del estado que sea propio o no propio desde un punto de vista de clase tiene que ver con que sea de los trabajadores y para proteger a los trabajadores no tanto con que sea exclusivo de nuestra nación pero efectivamente hoy no era ese el debate aunque detrás

la intencionalidad legitima sea ese y por eso hay que señalarla nosotros pensamos

de aquí tiene que salir algo con esta cuestión tiene que ser señalando porque modelo apuesta esta cámara de representación y no solo sobre volver a pedir las transferencias

y entrar a debate de quien tiene la culpa de que no se hayan transferido desde luego creo

de momento no la tiene lo que sí creemos y yo ofrecería a los grupos que se podría votar por puntos nuestra enmienda porque nuestra enmienda hay cuestiones que están de acuerdo unos grupos sí y otros no

pero hay cuestiones en las que sí estamos de acuerdo y por lo tanto pues sí algún grupo quiere

enmienda por puntos y veremos donde están los acuerdos y los desacuerdos sobre modelos concretos y no solo sobre la transferencia eskerrik asko

aunque los demás digan hay que tomar medidas y nadie quiera aprobarlas porque esperan que las aprueben otros que saben el sistema mientras ellos se dedican a hacer demagogia barata

señora castelo en este país la única rebaja de las pensiones que se ha producido ha sido gobernando el partido socialista obrero español a usted le puede gustar poco mucho regular

pero en fin los únicos que han bajado las pensiones ha sido gobernando el partido socialista

y el gobierno nos ha remitido el mes pasado un informe y en ese informe reconoce que la sentencia del año ochenta y nueve pues en fin como que esto que se ha estado planteando siempre desde el nacionalismo

porque viene en el propio informe cuando habla de jurisprudencia claro pero luego cuando hace valoración ese informe nos dice que debe asumirse porque sí que el desarrollo legislativo y la ejecución en la materia correspondiendo por tanto la gestión de las distintas prestaciones del sistema de la seguridad social

y ya está es decir eso sí me gustaría que me lo contestará señora gorospe

el sistema es deficitario en el país vasco por la crisis que no que no

antes de la crisis hace ya más de once años hace más de once años si los vascos al fondo cuando se crea el fondo si prácticamente no hemos aportado siempre hemos sacado

es viable en españa en el conjunto de españa y aquí en el país vasco

salvo que usted compense con recaudación de impuestos esos tres mil y pico millónes de euros que faltan al año lo cual implica que tiene que recaudar de todos los impuestos un treinta y cinco por ciento más de lo que está recaudando ahora y se lo dije hace año y medio pero no nos dicen de quién y dónde

claro y dice por qué no se hizo esta transferencia cuando gobernaba el señor lópez con nuestro apoyo hombre

materializar las políticas activas de empleo que ustedes se negaban a recibir durante quince años le tengo que recordar

que gobernaba el señor zapatero en madrid que estaba en minoría

llega a un acuerdo para la transferencia se meten ustedes por en medio para retrasarlo todavía más e incluir las bonificaciones de los contratos

le recuerdo esto del fuero y el huevo que tuvimos esta discusión aquí cuando yo les decía que eso nos iba a costar cincuenta millónes de euros al año no preferimos el fuero y no el huevo

trescientos millónes euros nos ha costado desde entonces la broma eso sí enredaron en madrid lo que no está escrito con el señor zapatero y nos dice oiga y el señor lópez duró tres años

a las que ustedes sistemáticamente se llevaban negando a recibir la última comunidad autónoma de toda españa ocho años antes la penúltima había recibido esas transferencia hombre reconózcanos

verdad el estatuto de autonomía y las transferencias con el partido socialista a instancia del partido popular y señora pinedo no sé si hay un error tipográfico pues en el corte y pega habrá que revisar el corte y pega para si

solo decirle una cosa en este tema dios no manda cómo debe hacerse la transferencia

tampoco voy a sacralizar ni la constitución ni el estatuto ni el tribunal constitucional

pero cuando usted me pregunta que qué problema tenemos con su sistema que porqué nos negamos pero oiga es que yo quiero que mi madre me siga invitando a comer a casa

porque si algún día aceptara su sistema mi madre se quedaría sin pensión sí sí sí

y todas las que están en la misma situación que ella y otros señores que estarán en la misma situación que

cómo no me voy a negar yo al desguace de propuesta que plantean ustedes de un sistema vasco de pensiones que es deficitario desde el minuto uno le he dicho antes que de dónde iban a sacar el dinero

pero ni ustedes ni estos señores tampoco el año pasado cuando hablábamos de este tema aquí nadie habla de cómo se pagan las cosas

los trabajadores y hace cincuenta años el país vasco tenía superávit

quebrado el sistema en españa en el país vasco y en todas partes no había ni un euro para pagar las pensiones no me hable de hace cincuenta años y cuando se resuelve el sistema y se crea el fondo
nosotros somos deficitarios y no aportamos y no aportamos amaitu mesedez

si llegamos a tener esa competencia que nos decía que no la tenemos por eso tampoco nos diga que se incumple el estatuto de autonomía cuando reconoce que no está pidiendo eso

habría que renunciar a ello eskerrik asko damborenea jauna castelo

ya lo siento pero no pertenecemos a un grupo que tengamos el tema mucho de la ideología religiosa metida en la vena

eh bildu a mí me ha parecido una bonita defensa del estatuto de autonomía del cumplimiento estatutario de la necesidad de cumplimentar

lo que pasa es que claro lo que usted está pidiendo después no es eso usted no quiere exactamente que completen las transferencias de lo que está hablando usted es de un sistema vasco de pensiones pues de lo como digo yo

aspiraciones que tienen ustedes como independentistas y que resulta muy contradictorio

que nos viene haciendo yo no sé si nosotros sabemos trocear y cepillar pero ustedes los de eh bildu han estado y de eso saben mucho durante muchos años

la verdad yo creo que la transferencia tiene que llegar nosotros somos firmes defensores de ello y lo tendrá que hacer como lo dice el estatuto y con un sistema que para nosotros tiene que ser un sistema público

interterritorialmente no sé si eso lo sabe usted entender interterritorialmente e intergeneracionalmente y por tanto lógicamente no podemos estar en la propuesta que usted realiza pero tampoco es verdad

con lo que el partido popular aboga aquí con el sistema público de pensiones porque alguien creó el fondo sí

también y como decía y leía yo ayer en un blog de algún catedrático de derecho sobre la seguridad social decía alabado sea el partido popular él lo crea él lo dilapida pues estupendo

para pagar servicios públicos una reforma fiscal para qué para generar más ingresos y no hacer recortes que fue usted

en el estado y aquí para generar más ingresos hay una medida sencilla y que tiene ustedes en la mano y es recuperar la negociación colectiva para reequilibrar el poder entre empresario y trabajador volver aponer en vigor los convenios colectivos volver a garantizar unos salarios dignos porque claro en este momento lo que ustedes han hecho con la reforma

en marcha fue simplemente cepillarse el marco de protección o el paraguas de protección que tenían los trabajadores y ahora tenemos trabajadores de dos velocidades

al derecho consolidado y aquellos que entran al albur de lo que las empresas quieran hacer y entre eso y que las reducciones y bonificaciones que ustedes midieron y este tema de la tarifa plana y todos para arriba y todos para abajo

le va a costar cubrir los gastos y si los gastos propios de la seguridad social en vez de pagarlos desde los presupuestos del estado y contra los ministerios sigue pagándose contra la seguridad social y esto es algo que se está diciendo en el pacto de toledo ese pacto de toledo al que ustedes les importó un comino saltarse en el año dos mil trece porque

pero eso le salva usted aquí en la tribuna pero lo saben perfectamente todos los pensionistas que están en la calle es decir

no cubre lo que decía el pacto de toledo que tenía que cubrir que era el ipc y ustedes se saltaron el ipc a la torera de forma unilateral y los que están bajando las pensiones desde entonces y hasta ahora son ustedes porque antes les servía también que el ipc iba a ser negativo pero es que ya no está siendo negativo

a dos mil veintidós y verá usted el corte y no lo digo yo si solo tiene usted que revisar un poco

reuniones que han tenido en el pacto de toledo y en el que estas cuestiones

poniendo en marcha y que es una de las cuestiones además que sabe usted que está artefactado en este momento el tema de llegar a un acuerdo en el pacto de toledo es exclusivamente

no pérdida adquisitiva de las pensiones podrá usted seguir diciendo aquí y mencionando a zapatero pero en este tema en el tema

en duda que fue el partido socialista quien creó el sistema que lo creó de una forma pública de reparto solidario y que vamos a seguir defendiéndolo y que no vamos a permitir esa conexión que ustedes están haciendo simplemente y lo sabe perfectamente porque tienen unos cálculos electorales y por eso no adoptan medidas ya

la primera vez que con crecimiento de empleo la primera vez que con crecimiento de empleo no se incrementan los ingresos de la seguridad social igual

diru eskuragarritasun banaketa a modo ilustrativo

kontutan hartu beharko duguna señor hernández bueno usted decía que quería hablar del modelo y en su no estamos de acuerdo planteaba

de poder votar por puntos no estamos de acuerdo en lo que intuimos que de lo que ustedes escriben están planteando en el primer punto no he bajado

pero se refieren a un sistema de previsión social no a un sistema público de pensiones no sabemos si están hablando de otra cosa ustedes se refieren también a un

que las negociaciones se desarrollan entre partidos en un ámbito de anormalidad institucional creo recordar que es exactamente la idea que ustedes dan

que usted hace además y sobre todo en cuanto al modelo también usted plantea un modelo de

hablando de un órgano que se crearía entre las instituciones el gobierno de españa la tesorería general de la seguridad social y el gobierno vasco

y nosotros en absoluto compartimos ese modelo porque cuando estamos hablando de transferencias

es de subrogación estamos hablando de sustitución y de hecho en la ficha que el gobierno vasco nos ha remitido en relación con esta competencia así lo dice gestión de régimen económico de la seguridad social en el ámbito de la comunidad autónoma dentro de su carácter unitario al respecto

mediante la subrogación de las instituciones autonómicas

ese es el escenario en el que entendemos debe desarrollarse ese es el modo que nosotros consideramos que debe realizarle la transferencia

cogestión y no estamos de acuerdo con lo que plantea también plantea que los miembros de la comisión mixta

vengan al parlamento vasco a dar cuenta de las negociaciones y

son representantes del gobierno de españa que a nuestro juicio no tienen ninguna razón de ser que vengan al parlamento vasco a dar explicaciones de cómo van avanzando esas negociaciones

compañeros y compañeras parlamentarias la verdad es que había pensado utilizar uno o dos minutos porque no siempre que uno tiene diez minutos tiene que llenar el tiempo porque muchas veces las palabras van por una parte y las ideas por otra

estamos contentos porque con esta iniciativa con esta proposición no de ley sobre la transferencia de prisiones el partido nacionalista vasco euskal herria bildu

elkarrekin podemos y el partido socialista de euskadi queremos solicitamos pedimos exigimos

y al gobierno central que inicien negociaciones para la transferencia de la gestión de las prisiones a la comunidad autónoma vasca el pp se lo estaba pensando luego nos comentara la parlamentaria nerea llanos lo que piensa y me iba a sentar porque he dicho

no molestes no pero como es un lio esto de la transferencia de prisiones

cinco brevísimas reflexiones la primera es que no es un capricho

la mayoría de la ciudadanía vasca hace treinta y ocho años ya se ha planteado para que se cumpla el estatuto

es impensable es molesto y por lo tanto en nuestra opinión es imprescindible que se cumpla la transferencia

que tenemos que andar con un poco de cuidado porque claro el estatuto y su cumplimiento es una ley orgánica

y dependiendo de los negocios que tenga el partido nacionalista vasco y el pp o el pnv en relación con me das te doy presupuestos transferencias cupos pues la gente se da cuenta y para la gente entonces

puede pasarle por la cabeza que las leyes las leyes orgánicas los derechos sociales o los derechos civiles son motivo de

es un lio porque se distorsiona la realidad jurídica del país la transferencia de prisiones es una ley orgánica que se cumpla la tercera reflexión es que la transferencia de prisiones no es el acercamiento de los presos de eta

reivindicaciones legítimas por otra parte que se tenían que haber hecho hace tiempo no agota la transferencia de prisiones estos asuntos estamos hablando de un colectivo de más de mil cuatrocientos presos y presas están en las prisiones vascas y posiblemente

fuera de la comunidad autónoma vasca estamos hablando de que

por haber cometido todo tipo de delitos desde pequeños robos

tengan la oportunidad de gestionar su privación de libertad en euskadi

este debate la cuarta reflexión es que realmente esto es un lio porque no despierta ninguna simpatía en la gente esto

inserción social es un lio no es sencillo mediáticamente el tema de la gestión de prisiones

a la privación de libertad no a vivir una situación indigna

muy difícil de manejar y mucho menos vulnerar las cuestiones básicas de la condición humana

las instituciones públicas y nuestro gobierno tenemos una importante responsabilidad en el cuidado de esas personas

en materia humanitaria es una oportunidad de mejorar las en ocasiones precarísimas condiciones de vida de estas personas por lo tanto más que una transferencia de carácter político para elkarrekin podemos es una transferencia

y quinto y último una ejecución penitenciaria que a nuestro juicio y el de los principales colectivos sociales con los que hemos consultado que atienden a personas presas deberían pivotar sobre dos bases la reinserción social de las personas presas y dejar la privación

en régimen cerrado de cumplimiento de penas como último recurso

señora consejera como en este mismo pleno no voy a insistir en el tema pero sin duda es una oportunidad

den valor añadido a nuestra capacidad gestión eficaz humanitaria y en base a los derechos civiles no es un tema de buenismo vacío de contenido es un tema de intentar captar los enfoques más avanzados de las sociedades más avanzadas

desde un enfoque humanitario para que la sociedad vasca se fije en que es posible gestiones de carácter humanitario en base a derechos civiles de las personas presas y para finalizar

realmente esto es un marrón no solamente el pp quiere o no quiere

el pnv no ha querido tampoco en muchos años la gestión de prisiones porque es un lio

sin embargo las posiciones que hemos acordado y que hemos firmado y que no tengo más que palabras de agradecimiento a mis compañeros y compañeras parlamentarios

y como este punto no tendrá un consenso básico político donde la mayoría de esta cámara dé aval político al gobierno central y al gobierno vasco para que inicien ya

en la sociedad vasca es un lio para ser atrevidos

y diseñar políticas en base a derechos que tengan que ver con la mejora de la condición humana eskerrik asko eskerrik asko

hasta la fecha los diferentes gobiernos de la comunidad autónoma vasca no han conseguido no han conseguido de ninguna manera han sido incapaces

sea una realidad se nos ha dicho desde el lehendakari desde el consejero erkoreka desde la consejera también

justicia que esta es una prioridad que es una prioridad del gobierno vasco que es una prioridad del acuerdo de gobierno lo que no sabemos es siendo una prioridad cómo se van a llevar a cabo las cosas para que esta prioridad sea una realidad y

parece que puede haber movimientos y digo esto porque

y yo lo que pido es y lo que planteo con esta proposición es que esto si instamos a los dos gobiernos a que hablen para esto

no sea una tomadura de pelo a los que estamos pensando y a las que estamos pensando que efectivamente esto

adelante y por qué digo esto pues porque de repente me preocupan oír cosas como las que

solicitó apoyo a este parlamento y a la sociedad para conseguir que la transferencia esta se hiciera

pues me preocupo y digo bueno por qué pide apoyo será que ya esto que nos ha estado diciendo

será que hay que negociar esto a través de otra cosa será que necesita apoyo para luego

y hoy va a tener apoyo va a tener apoyo no solamente el gobierno vasco sino que también vamos a instar al gobierno del estado pero en este contexto nosotros sí que queremos decir

lo que está ratificando es su decisión de asumir con responsabilidad esta cuestión no solo como ha venido haciendo en todos los debates con propuestas sobre la misma para el desarrollo de una nueva y diferente política penitenciaria sino además apoyando esta enmienda para que al final se negocie se acuerdo y se consiga traer

penitenciaria a la comunidad autónoma del país vasco y por qué porque entendemos que esto permite dotarnos de herramientas importantes en la creación de un estado euskal herria bildu

hori jakinda ere los independentistas las independentistas no

a adquirir todas las herramientas posibles para hacer después lo mejor que podamos que estas transferencias vayan adelante

creemos que el sistema de ejecución penal tiene que ser diferente y planteamos además la otra forma en que se tiene que hacer

pues tras el debate de la transferencia de la gestión económica de la seguridad social toca ahora verdad debatir una pnl sobre la transferencia de la competencia penitenciaria

pues serán casualidades de la vida pero es que hacía casi nada tres meses y medio que habíamos debatido sobre política penitenciaria y habíamos participado y se estaban poniendo en marcha otra serie de herramientas no entonces todos los grupos tuvimos oportunidad de exponer nuestra posición

pues tendrá que consistir fundamentalmente en reiterar la posición de los socialistas con respecto a esta materia no les decía entonces y les repito ahora y sé que coincidimos en el planteamiento que nosotros defendemos una política penitenciaria flexible

y de los condenados que cumpla con el objetivo fundamental que está previsto en la constitución española en su artículo veinticinco y que no es otro que el de la reeducación y la resocialización

en la agenda la transferencia de la gestión de las prisiones en euskadi

inequívoca del partido socialista de hacer efectivo el cumplimiento íntegro del estatuto de gernika que se recoge literalmente en el acuerdo firmado por el partido nacionalista vasco

a la reclamación y negociación de las transferencias que el gobierno vasco identifique como pendientes de realización otorgando un lugar destacado a dos de ellas centros penitenciarios y gestión del régimen económico de la seguridad social

interno y externo porque eso también comparto lo dicho por el portavoz de podemos con la necesidad de pedagogía hacia el exterior

esta materias de otras materias de gestión y los socialistas hemos pedido estar al frente

integral una verdadera política social y de rehabilitación y en lo que podamos y nos competa así será

en los centros de nuestra comunidad este orientada a garantizar sus derechos a la salud a la educación pero también su derecho a la reinserción y me parece importante aclararlo como ha hecho usted y centrar el debate porque cuando logremos acordar esta transferencia la política penitenciaria seguirá siendo competencia del gobierno

y para evitar las tentaciones reiteradas de quienes quieren mezclar políticamente las dos cuestiones hay que aclarar que lo que trata esta transferencia es de que la comunidad autónoma del país vasco la organización de centros penitenciarios y centros de inserción social radicados en su territorio que en la actualidad dependen de la administración penitenciaria de la administración general del estado

organización régimen funcionamiento planificación e inspección de las instituciones penitenciarias ubicadas en la comunidad autónoma la planificación y construcción de centros administración y gestión patrimonial de los inmuebles organización del trabajo remunerado de la población reclusa así como la ejecución de medidas alternativas en prisión y las actividades de reinserción y esto es y no otras cuestiones lo que abarca esta competencia

sobre esta materia más que político no queremos un debate sobre lo que quiere una parte de la población reclusa

es en programar medidas resocializadoras para todos los presos y no para presos en concreto es más lo dijimos entonces y lo repetimos ahora

porque los debates públicos se han focalizado en una parte de la población reclusa el objetivo

más menos compartido en este arco parlamentario de cuál tiene que ser y es que sea cuál sea la razón que conduce a alguien

lo tiene que hacer reconociendo su error y con la firme voluntad de no volver a delinquir y los socialistas sabemos que estas son cuestiones de las de la intervención social y las prisiones

las que están específicamente orientadas a la reinserción de población reclusa porque a pesar de que la administración autonómica aún no tiene la competencia transferida

y hay que recordar que a través de los convenios que los socialistas firmamos hace dos

fuera del ámbito penitenciario el ejecutivo de euskadi es de facto responsable de la atención de la población reclusa y de su reinserción lo que nos va a permitir el traspaso de esta competencia

de hacer una política de intervención integral en todos los centros penitenciarios de nuestra comunidad por eso insistimos tanto en el anterior punto como en este en exigir el cumplimiento íntegro del estatuto y para nosotros algo tan serio

con el partido nacionalista y venimos defendiéndolo

desde siempre queremos que las conversaciones previstas entre los gobiernos de españa y euskadi no queden postergadas por cuitas partidarias y exigimos desde luego el cumplimiento del estatuto y de la constitución sin perjuicio de las modificaciones que posteriormente se podrían realizar muchas gracias

como se ha comentado no es una iniciativa nueva en un doble sentido

y en segundo lugar porque en múltiples ocasiones como luego detallaremos se ha debatido en esta cámara

y exigencia de que se transfiera a euskadi la competencia en materia de instituciones penitenciarias no obstante y a raíz del reciente informe realizado por el gobierno vasco de actualización de las transferencias pendientes

nabarmendu beharra dago euzko abertzaleak taldearen posizioa beti izan dela berbera y nuestra posición como decía ha sido la misma durante décadas

como base para el desarrollo de nuestro autogobierno reconocido y para avanzar en un nuevo marco jurídico político de futuro decía el señor uria que es un marrón de la política no es fácil lo fácil como dice un amigo mío lo hace cualquiera aquí de lo que se trata es de hacer realidad

y señor uria no tenga dudas de que el pnv sí ha querido y ahí están los hechos como luego también mencionaré desconozco dónde estaba usted entonces y cuál era su posicionamiento

del país vasco repito corresponde a la comunidad autónoma del país vasco la ejecución de la legislación del estado en las siguientes materias y la primera que menciona es la legislación penitenciaria

repito competencia exclusiva en las siguientes materias apartado catorce

y tutela de menores penitenciarios y de reinserción social conforme a la legislación general en materia civil penal y penitenciaria estatutuak ez du

artikuluaren arabera y a pesar de este claro y diáfano panorama legal y de las incontables peticiones que se han realizado en las últimas décadas exigiendo el cumplimiento de esta ley orgánica

nos podemos remontar al veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y siete hace más de treinta años cuando este parlamento aprobó por primera vez una proposición no de ley con el voto del pnv también señor uria

la negociación de esta transferencia y el gobierno vasco con fecha uno de febrero de mil novecientos ochenta y ocho liderado por el pnv también se dirigió al ministerio

después esta cámara ha aprobado por unanimidad por unanimidad en mil novecientos noventa y tres

y en mil novecientos noventa y cinco las prioridades establecidas para la negociación también con el voto del pnv señor uría entre las que se encontraba la transferencia de prisiones posteriormente se ha reiterado esta petición en muchas ocasiones y hoy nuevamente volveremos a hacerlo y el gobierno vasco

en varios acuerdos y más recientemente el propio lehendakari en persona ha solicitado también como aquí se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones

el inicio de las negociaciones conducentes a la transferencia de dicha competencia

las iniciativas presentadas por los nacionalistas vascos en las últimas décadas la última tramitada es una propuesta de resolución presentada por el pnv en el debate sobre el estado de la nación en dos mil catorce que era la propuesta de resolución treinta y nueve con el título transferencia prisiones a la comunidad autónoma del país vasco y que lo que decía es que instaba al congreso al gobierno a la transferencia de la competencia exclusiva en el ámbito de las estructuras penitenciarias y a la competencia de ejecución de la política penitenciaria en virtud de las previsiones

pues resulta que esa propuesta de resolución fue rechazada con los votos del partido popular

y curiosamente de izquierda unida hoy integrado en la coalición del grupo proponente esperemos que cuando quieran tramitar la proposición no de ley presentada en el congreso el pasado once de enero

confiamos en sus facultades conciliadoras y aunadoras para que

de este tema no tenga duda señor uria y señora goirizelaia del compromiso del pnv en esta materia

sigue negándose traspaso el gobierno del pp está incumpliendo la ley está incumpliendo la constitución y está incumpliendo el estatuto de autonomía

lo cual entendemos que no tiene ninguna justificación y lo más grave como aquí se ha comentado creo que la señora castelo o

lo más grave es que no tiene ninguna repercusión o consecuencia ni jurídica ni política a dicho incumplimiento como decía antes la posición del pnv en esta materia siempre ha sido la misma y una vez más lo llevábamos en el programa electoral

del pasado año y el acuerdo de gobierno entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista para la presente legislatura en el apartado denominado más y mejor autogobierno tras la enumeración de las transferencias pendientes ahora actualizadas en treinta y siete

la reclamación y negociación de las transferencias relativas a los servicios penitenciarios y a la gestión del régimen económico de la seguridad social

y que es un objetivo prioritario de esta legislatura por lo tanto nuestro grupo no va a dejar de reivindicar y reclamar la transferencia de prisiones a euskadi y para ello

será necesario negociar con el gobierno español esté quien esté nos guste más o nos guste menos será el que esté elegido en cada momento por la ciudadanía y el que los grupos parlamentarios permitan o aúpen a que así lo sea y valoramos muy positivamente la incorporación de otras fuerzas políticas algunas que no existían

a esta demanda histórica valga la redundancia por nuestra parte

quizás la novedad es que la izquierda abertzale se ha sumado de manera decidida a la reclamación histórica nacionalista del traspaso de esta competencia lo cual

y le damos la bienvenida al grupo de los que estamos reclamando la transferencia de prisiones desde hace mucho tiempo sí que es cierto que con poco éxito hasta ahora

usted sabe que nosotros cumplimos lo que décimos y para hacer cosas diferentes decía que no sea para cosa diferente la reivindicación es muy clara estatuto

y ficha número treinta y uno de la actualización reciente realizada por el gobierno vasco gaur

estatuto del que el pasado veinticinco de octubre se cumplieron treinta y ocho años de su aprobación

democrática y pacífica en un referéndum y que goza también se supone del respaldo de las instituciones del estado

es que se cumpla es un tema de voluntad política es triste y lamentable que este parlamento tenga que instar a un gobierno al gobierno español que se dice democrático que cumpla y aplique la ley antes decía el señor damborenea que no está ahora

precisamente eso es lo que pedimos hoy aquí es muy llamativo por cierto que quienes continuamente están en los medios de comunicación y en ámbitos institucionales apelando al estado de derecho y reclamando el cumplimiento de la ley sean quien incumplen esta

y que se cumpla ya no se pueden incumplir consciente y deliberadamente el ordenamiento jurídico vigente

exigimos el cumplimiento del estatuto el cumplimiento de la ley fuera de toda coyuntura política no es más que pedir al gobierno español que cumpla la ley que atienda a una reiterada petición de dialogo y que además es más que razonable otras comunidades autónomas como cataluña

y la apertura de una negociación en el marco de la comisión mixta de transferencias de igual a igual que culmine con un acuerdo

únicamente haría falta un juzgado más de vigilancia penitenciaria por tanto lo dice la ley el estatuto que es la ley suprema de nuestra comunidad autónoma no hay dificultades técnicas para llevarlo a cabo otras comunidades autónomas se han transferido solo falta voluntad política

y cuantos más estemos en esta posición mucho mejor compartimos lo que decía el señor uria de que es necesaria la competencia para poder hacer otra política penitenciaria más humanitaria y orientada hacia la reeducación y la reinserción social de las personas privadas de libertad lo que se ha intentado es lograr el mayor consenso posible sobre la materia buscando el mínimo común denominador

dejando al margen otros aspectos importantes también pero que nos podían separar o alejar

buenas tardes ya a todos pues sí volvemos a hablar en esta cámara de la transferencia de prisiones

de lo que estábamos hablando era de la transferencia de la política penitenciaria

es verdad que en la petición se ha sido contumaz

que los españoles no han tenido la fortuna de que el partido popular

el partido socialista y supongo que también debieran de dirigir su mirada allí y también estará conmigo que ha sido un tema sensible cuando menos

parte de las argumentaciones que dije aquí hace cuatro meses porque hace cuatro meses que debatimos esta cuestión

hoy aquí entonces para el grupo hoy proponente era imprescindible imprescindible la creación de una ponencia para debatir la política penitenciaria que se iba a realizar aquí

no quiero decir nada para quien trajo la iniciativa en ese momento que era eh bildu por parte de su portavoz entonces en ese tema y hoy también aquí

decía antes la señora gorospe que ahora no está que iba a dar un titular con relación a la trasferencia de la seguridad social

podría decir que con relación a elkarrekin podemos y a eh bildu ha habido un viraje en las posiciones pero concretamente con eh bildu iría más el titular sería un giro copérnico

copérnico porque han pasado de reclamar la legislación penitenciaria a reclamar los servicios penitenciarios que es lo que han firmado es lo que han firmado reclamar

es lo que se puede reclamar y siguen pidiendo la competencia como

fuera ya la panacea para que todo funcionara de forma absolutamente diferente pero sin embargo no se fijan ni exigen

aspectos de cuestiones que se llevan a cabo

son competencia de la comunidad autónoma como se ha dicho aquí ya se dijo entonces pero yo hoy lo quiero reiterar aquí porque en el ámbito sanitario en el ámbito educativo y en el ámbito social las instituciones vascas ya intervienen el real decreto

porque con un gobierno del partido nacionalista vasco no el real decreto ochocientos noventa y cuatro barra dos mil once regula la integración de los servicios sanitarios de las prisiones

y se establece que la prestación sanitaria depende de los servicios médicos de la comunidad autónoma reservándose el estado únicamente aspectos de alta inspección

es decir que lo que se viene a restablecer en ese real decreto es que la comunidad autónoma del país vasco ejercerá la asistencia sanitaria en esos centros penitenciarios

firmó un convenio de colaboración institucional con el departamento de justicia e interior del gobierno vasco mediante el cual a modo de encomienda de gestión

departamento pasaban a realizar las gestiones de tramitación seguimiento y ejecución de penas y medidas alternativas dictadas por los juzgados de lo penal del país vasco por otros juzgados del resto de españa si los penados residían

por lo tanto el control de las penas alternativas están gestionados por ese servicio por tanto las instituciones vascas pueden participar pueden atender las necesidades de atención a las personas privadas de libertad

y es posible coordinar esas competencias de la comunidad autónoma vasca como digo en aspectos sanitarios de educación de empleo sociales luego señores de podemos y señores de bildu ustedes podían pedir cuenta al gobierno vasco por cómo ejercen esas competencias que sí tienen atribuidas cómo se ejerce la sanidad en las cárceles vascas

los programas sociales cómo se hace el cumplimiento de las penas alternativas es más hay un informe del ararteko que se refiere

de recomendaciones también en este sentido

pero ustedes no ustedes ponen el foco en eso no

no ponen el foco en lo que ya está llevando a cabo el gobierno vasco y si lo hace bien o lo hace mal que según el ararteko hay cuestiones

no ponen el foco en eso y yo tengo que reconocerle le decía

que les atrae a sus posiciones a las posiciones de mirar hacia madrid

hacia madrid y mientras tanto eluden que se hable de si se hace bien o se hace mal de aquello que sí tienen competencia

cataluña se realizó en mil novecientos ochenta y tres se amplió después en el ochenta y seis y en el estatuto de cataluña actual el que trae origen de la redacción dada en dos mil seis no sé en la república catalana qué dirían adopta

pero no se crea que porque tengan la competencia están ajenas a críticas en absoluto

el funcionamiento a pesar de que la competencia es autonómica

bastante que desear con huelgas de funcionarios incluidos porque lo importante señor zorrilla más importante que tener la competencia es tener gestores

y ustedes ustedes se pasan la vida reclamando competencias para no tener que dar cuenta de la deficiente

haré referencia en una de las preguntas que tengo en el pleno de control que se celebrará mañana porque se lo he dicho en muchas ocasiones la competencia no es la panacea para el buen funcionamiento porque le digo que las tienen las tienen en el ámbito educativo en el ámbito social en el ámbito

y desde luego y a juicio de lo que dice el ararteko hay ámbitos de mejora en ellos es una transferencia que está pendiente sí pero serán el gobierno vasco y el gobierno central los que tendrán que acordar el cuándo y el cómo y no lo va a ser ni porque lo pida bildu ni porque lo pida podemos ni porque lo pida el partido socialista

será el cómo y el cuándo cuando lo decidan los dos gobiernos nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos

muy breve yo parlamentaria llanos

apoya o no la enmienda no le he entendido muy bien

pero para qué estamos los parlamentos que es una pregunta que no es tontería igual cuando acabemos la sesión seguimos hablando del tema que para qué estamos los parlamentos

para dar aval político a nuestro gobierno para desautorizar a nuestro gobierno

de los grupos sociales para qué está nuestro parlamento

a usted dice claramente que esto es una negociación entre el gobierno vasco y el gobierno central de tú a tú para

eso es lo que dice la proposición si somos gente muy humilde nerea llanos bien

yo no tengo más que agradecerle la pasión que ha puesto en la intervención

se crea las cosas que dice cómo me gustaría a mí el

o de comisión de seguimiento señora presidenta no sé si habrá que hablar de esto algún día para ver las cosas que no se cumplen que propone este parlamento

por mayoría cuando el parlamento por mayoría ha tomado una decisión que no se cumplen que nadie las cumple una comisión de seguimiento

uno de cada grupo la presidenta claro que es hace un año cuando hemos

claro que el pnv ha tomado iniciativas tanto a nivel mediático en los últimos meses como a nivel de pacto de gobierno no hay ningún avance a nosotros nos parecía que cierto aval político cierto consenso político que la cámara estuviese de acuerdo casi al cien por ciento sería un buen aval político no solamente mediático sino para que nuestros gobiernos reflexionen o no valen para nada los consensos políticos que aquí logramos

de todas maneras muy agradecido parlamentario zorrilla parlamentaria llanos

parlamentaria castelo sin duda es una buena iniciativa el empezar con cierto consenso perdón empezar

parece que empieza todo con nosotros eso le cuesta decir mucho al psoe empieza todo con nosotros no hombre no

como la transferencia de la gestión de prisiones que no solamente es esencial sino que nos permitiría dar valor añadido al desarrollo

y doce punto uno del estatuto de autonomía no quiero extenderme solamente dar las gracias también a jone goirizelaia la parlamentaria ha dejado pelos en la gatera para firmar esta enmienda yo creo que ya lo comentó el parlamentario

ya me gustaría a mí que en un tema complejo

haya este nivel de consenso gracias a todos inclusive a la

de justicia y de trabajo porque no solamente vamos a evaluar

en un conjunto de comparecencias que ya hemos solicitado y donde abordaremos

tenemos en la agenda sanidad la educación las políticas sociales y obviamente las propuestas de los nuevos modelos de gestión

de la organización y penitenciaria y además el desarrollo de la ley general penitenciaria que ya lo ha explicado
el parlamentario zorrilla muchas gracias a todo el mundo eskerrik asko uria jauna

la verdad es que muy bien que nos haya explicado

la amplitud que tiene y todas las cuestiones que podemos tener y sobre las que tendremos que tratar y debatir

que me había leído ya eso antes y que ya lo conocía sino igual para alguien que yo creo que vive en otro mundo y que está en otra galaxia porque cuando

en concreto de las cuestiones esas pues se entere bien

y que supone las transferencias y sobre qué cosas estamos hablando hay una cosa que me ha interesado de lo que ha dicho ha hablado usted de que usted quería hacer un debate social

también a nosotras nos importa ese debate por eso hemos planteado precisamente ese debate lo intentamos hacer a través de una ponencia

en la comisión de justicia y trabajo que nos va a permitir hacer ese debate social y esperamos que en ese debate social pero sobre todo en las conclusiones de ese debate social

el apoyo y la colaboración del partido socialista porque se trata de hacer las cosas mejor y de hacer una política penitenciaria propia diferente y nueva

pues me alegro que me dé la bienvenida nos damos aquí todas las bienvenida usted me aplaude yo le aplaudo perfecto

y vamos a ponernos a trabajar que es lo que queremos está muy bien

en la que alguien del partido nacionalista vasco venga y nos cuente otra vez todo lo que hemos hecho y llegamos a la conclusión de que al final no tenemos nada en las manos todavía ya

vamos a ponernos a hacer las cosas y vamos a avanzar y yo creo que esta propuesta de hoy este acuerdo pues es una base importantísima

vamos a ver si lo conseguimos señora llanos mire hay una película que no sé si ha visto que es un señor que está metido dentro de una bola porque tiene una enfermedad y no puede salir pues yo cuando le oigo hablar a usted

y que no se lee las cosas como se plantean que usted viene con lo que tiene que ser decidido que me parece muy bien y le importa bastante poco lo que haya pasado y lo que pasa aquí nadie ha dado ningún giro copernicano ni ninguna voltereta lateral

se discutía en el mes de junio una propuesta concreta sobre un nuevo modelo de política penitenciaria qué es lo que queremos hacer y no se hablaba de transferir la política penitenciaria que hace el pp que no la queremos que no la queremos para nada que no nos gusta que no es buena que deja las cárceles como están que permite que las personas

y que lo hace conscientemente eso no lo queremos y planteamos cada uno nuestro modelo

eso se tiene que hacer con transferencias y se pueden ir haciendo cosas también se pueden ir haciendo cosas y mire usted me dice una cosa

de lo que decía el ararteko y de que el ararteko hablaba

porque el ararteko decía que o que si nos lo habíamos leído mal o que nos lo leyéramos bueno me da igual ha hablado usted del informe del sí igual tampoco lo ha escuchado bien pero mire

página catorce del mismo y hablando de una de las cosas que usted ha mencionado de la salud sabe lo que dice por ello insistimos en la necesidad

el ararteko dice lo que usted ha dicho que no dice bueno pues esto es de lo que estamos hablando

del reino de españa y el gobierno vasco se tienen que poner de acuerdo

que inicien negociaciones para ponerse de acuerdo eso es lo que dice con lo cual

lo que estamos diciendo qué parte de lo que dice la propuesta no ha entendido espero que nos lo explique porque yo si no lo único que deduzco es que su posición es no a esta cuestión y no a esta cuestión desde su posición de defensora de la legalidad de defensora de la constitución

y plantear las medidas que se plantean pues queda bastante en entredicho y eso sí que es

en el vacío de esa legalidad que ustedes dicen que defienden

voy a decir breve y espero no agotar no agotar el tiempo porque a veces cuando se dice breve es cuando se agota justo todo el tiempo bueno hemos llegado a un acuerdo entre

resocialización y una política más humanitaria e integral era lo correcto

sí que es verdad que podemos desplegar servicios señora llanos en base a acuerdos y convenios previos que hemos tenido pero la competencia en esta materia está recogida en el estatuto de gernika que es una ley orgánica y que hay que cumplirla no son la panacea no será la panacea pero es lo que establece el estatuto de gernika

solicitar que se culmine el proceso de transferencia y que se complete el estatuto

una conjunción de voluntades entre cuatro fuerzas políticas significa que ninguna de ellas renuncia a ninguna posición y además algunos de los portavoces que han bajado lo ha dicho es decir nosotros lo entendemos como un pacto intermedio

cada uno tiene sus objetivos o la defensa de sus intereses en política y nosotros llegamos a acuerdos

que haya un aval político al gobierno para que inicie estas reclamaciones y para esa prioridad que desde los grupos socialistas y nacionalistas le hemos dado a esta transferencia pues bienvenido sea pero también es cierto que yo prefiero que sobre este tema sobre la gestión de este tema

que no político porque a nosotros lo que nos interesa es la puesta en marcha de servicios orientados a la resocialización de la población reclusa y no a otras cuestiones que se podría en el debate político perfectamente perjudicar de todas formas y ahora sí que termino señor uria si a usted le gusta saber

el gobierno con respecto a las proposiciones de ley que salen aprobadas por este parlamento le recomiendo la lectura del informe de seguimiento de cumplimiento de las proposiciones de ley

nos dan todas las justificaciones habidas y por haber pero ahí está el control no necesitamos otro control más que la lectura de ese informe que de forma periódica

hay una cuestión que tampoco hay que olvidar y es que mejor dejamos él porqué hemos llegado a este momento sin la transferencia de la política de prisiones

en este tema no han sido para nada iguales por eso decía mejor debatimos desde el punto de vista social que desde el punto de vista político eskerrik asko castelo

señor uria es raro que se le haya olvidado a la señora castelo hacerle esa puntualización

en esta cámara y bueno yo le decía desde allí que no es necesario que no es necesario una comisión de seguimiento porque la pasada legislatura a iniciativa del parlamentario del partido popular carmelo barrio se aprobó por unanimidad que el gobierno

de la mesa el informe correspondiente al primer periodo de sesiones

decía que vamos a dejar de aplaudirnos y vamos a ponernos a trabajar no se equivoque guk beti egunero

algunos y algunas llevamos cuarenta años trabajando en esta y otras muchas materias y sin tener la transferencia el gobierno vasco lleva muchos años trabajando para mejorar desde todo punto de vista señora llanos

en esos principios que mencionábamos de reeducación y de resocialización intentando ser respetuosos con los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad

eta gainera ezinbestez premiazko den espetxeen transferentziari lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley

únicamente que se cumpla la ley señora llanos esa sacrosanta legalidad vigente a la que ustedes recurren cuando le interesa le trasladaría como tiene el último turno

de respuesta la pregunta que le hizo nuestro parlamentario aitor esteban en el congreso al señor rajoy

porque díganos señora llanos qué parte de la enmienda transada

nos ponemos en lo peor igual nos sorprende qué parte de la enmienda transada no le gusta qué parte no le parece legal o qué parte atenta contra el orden constitucional tantas veces alegado recientemente en cataluña porque lo planteado para aprobar es el parlamento insta al gobierno vasco y al gobierno de españa a los dos a que inicien el diálogo

de la comisión mixta de transferencia donde hay una relación de bilateralidad

al objeto de llevar a cabo un proceso de negociación otra palabra también curiosa que culmine con un acuerdo

qué parte de eso cree que no se puede aprobar o le dificulta

cuál es el acuerdo que se pretende pues el que dice la ley usted mencionaba el estatut de cataluña tras la reforma del dos mil seis el artículo ciento sesenta y ocho

b la totalidad de la gestión de la actividad penitenciaria en cataluña especialmente la dirección organización régimen funcionamiento planificación y la inspección de las instituciones penitenciarias de cualquier tipo situadas en cataluña cien la planificación construcción y reforma

la administración y gestión patrimonial de los inmuebles y equipamientos adscritos a la administración penitenciara

reclusa así como la ejecución de las medidas alternativas en prisión y las actividades de reinserción es un artículo del estatut que no fue laminado digamos utilizando esa expresión que se ha utilizado algo similar antes

de lo que el orden constitucional permite con esto nos daríamos con un canto en los dientes inicialmente nosotros y creo que los que hemos firmado esta propuesta

está en la ley por tanto pedimos y exigimos respeto y cumplimiento de la legalidad vigente y lo exigimos

desde un mayoritario respaldo democrático de sesenta y seis de setenta y cinco diputados diputadas el ochenta y ocho por ciento de la cámara

no es suficiente y además ya no les vale el comodín del terrorismo señores y señoras del pp sean valientes y exijan a su gobierno que respete y cumpla la ley sean valientes como lo fue el señor maroto en la pasada legislatura con el tema del cierre de garoña

exijan a su gobierno que respete y cumpla la ley nosotros hoy nuevamente se lo exigimos los que vivimos en euskadi debemos defender nuestro autogobierno su gestión y desarrollo y los poderes públicos vascos están comprometidos

garantizar como decía antes la reeducación y la reinserción social besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

señor zorrilla a usted solamente le voy a decir una cuestión

ha venido a reiterarnos lo mismo que ha dicho en la primera intervención hombre llamar al terrorismo comodín

el terrorismo desde luego ha sido algo que

y que ha causado mucho sufrimiento en euskadi y en el resto de españa pero se lo decía y al

que no ha estado gobernando ininterrumpidamente el partido popular que yo comprendo que a muchos

que alguna vez el señor zapatero estuvo gobernando en españa pero que también lo olviden los propios señores del partido socialista pues que se hubiera dado la transferencia completa en ese momento pero no se dio y ahora sin embargo

pero yo me remito a la contestación que en su día le daría el señor rajoy al señor esteban y usted decía señor uria que para qué estábamos aquí pues mire los parlamentarios vascos estamos aquí para controlar al gobierno vasco fundamentalmente para controlar al gobierno vasco

para traer las iniciativas de la sociedad vasca y yo puedo estar de acuerdo con usted que la situación de la población penitenciaria claro que es importante

ese derecho constitucional de la reinserción y la resocialización es importante pero también le diré no es una prioridad de la sociedad vasca no es una prioridad puede ser una prioridad para el gobierno vasco el reclamar la competencia pero desde luego

en una encuesta cuáles son las prioridades de la sociedad vasca y usted lo decía

no es una de ellas ello no quiere decir que no debamos debatirla y le diré me ha invitado usted a la comisión de justicia formo parte de la comisión de justicia anteayer estuve con usted en esa comisión larga por cierto y señora goirizelaia con lo del ararteko me referiré ahora porque

señora goirizelaia la película se llamaba el chico de la burbuja la conozco perfectamente

para burbuja la que han vivido su grupo y sigue viviendo porque de verdad que usted me venga a dar a mí lecciones

pero vamos aplíquesela ustedes que todavía siguen

y sin respetar un derecho constitucional como es el derecho a la vida que siguen sin condenar esa vulneración y ustedes vienen aquí al resto a darnos lecciones de constitución y de ley ya le digo aplíquese la frase

es que su grupo los ha dejado todos todos yo comprendo aplausos aplausos los de los señores del partido nacionalista vasco con las orejas tienen que estar aplaudiendo

por activa y por pasiva pero no es competencia ni nunca va a ser competencia de la comunidad autónoma de euskadi porque es competencia estatal competencia exclusiva del estado según

es competencia exclusiva del estado y ustedes eso es lo que reclamaban y en esa iniciativa y en su enmienda porque si tan claro lo tenían

directamente a la propuesta de elkarrekin podemos pero no ustedes presentaron una enmienda con postulados muy parecidos a los de su

pidiendo una legislación penitenciaria y hoy aquí no hoy aquí eso como le digo pelos en la gatera no se los han dejado todos y yo no decía que no se hubieran leído el informe del ararteko seguro

claro pero se han leído o han aducido aquí una parte que efectivamente pone eso

la contratación de internos e internas en tercer grado por medio de los programas de fomento de empleo existentes en la comunidad autónoma del país vasco es uno de los aspectos

y que sin embargo ha sido de escasa aplicación en este momento competencia de euskadi de escasa aplicación

que el ararteko en ese informe también dice se puede afirmar que el citado convenio sigue siendo en buena parte

un instrumento cuyas potencialidades han sido todavía poco desarrolladas y yo les decía

no y eso lo dice también en ararteko como dice que no les voy a

comparativos con el resto que hay que diversificar la actual oferta educativa que todo eso es competencia en función de ese convenio de nuestras instituciones y que hace una serie de alusiones en ese informe el ararteko que son competencia y ustedes eso

lo olvidan tanto elkarrekin podemos como eh bildu y por supuesto ya le digo aplausos con las orejas con las orejas

solo miran a madrid y mientras tanto lo que hace el gobierno vasco parece no interesarles y por cierto vamos a votar en contra eskerrik asko llanos andrea

y en el proyecto de presupuestos presentado la dotación económica del departamento para gastos corrientes incrementa un uno coma ocho por ciento sin embargo la aportación ordinaria a la upv ehu solo se incrementa en un uno coma tres por ciento desde luego como declaración de intenciones es muy clara además los presupuestos del dos mil diecisiete se recogía que la previsión de los contratos programa para el dos mil dieciocho debía de ser de veintidós coma cincuenta y cuatro millónes de euros

ha rebajado esta cifra en uno coma cuatro millónes de euros también

la aportación ordinaria a la upv ehu para el dos mil dieciocho se prevé bajar en un cinco coma seis por ciento respecto a la aportación del dos mil diecisiete es decir no es solo que no se suba

en este capítulo también y aunque los presupuestos del dos mil diecisiete se recogía que la previsión de los contratos programa para dos mil dieciocho debía de ser de nueve coma doce millónes de euros

rebaja esta cifra a siete coma uno millónes de euros es decir una rebaja respecto al acordado de dos millónes de euros ulertezina da

beharrezkoa duela urtez urte aldatuko ez diren aurrekontu egonkorrak izatea eta inbertsioa handitzea pero también quiero recordar las palabras de la rectora nekane balluerka en el acto de inauguración del curso académico sobre investigación y decía y son palabras textuales en este sentido puede ser ilustrativa la exposición de algunos datos extraídos del eustat y del eurostat con referencia al año dos mil quince

un uno coma ochenta y cuatro y el del estado español un uno coma veintidós

las cosas cambian considerablemente en este caso el gasto en euskadi cero coma treinta y cuatro por ciento se asemeja al del estado español también del cero coma treinta y cuatro por ciento y se queda muy por debajo del de la unión europea cero coma cuarenta y siete por ciento es decir

encontramos un margen de mejora al que podemos y creo que debemos aspirar en euskal herria son otros agentes y sectores los que ejecutan una parte importante de lo que en europa en cambio

y considero que esto es algo que debería ir corrigiéndose para poder así acercarnos a los estándares europeos que nos sirven de referencia las consecuencias de una

benéficas desde luego como rectora decía balluerka

financiero suficiente y estable que garantice la universidad un desarrollo cabal de su trabajo suficiencia financiera y estabilidad económica y también jurídica son las claves para asegurar el futuro de la universidad eta finantzazioaz ari garela ezinbesteko ere da gogoratzea

en la presente ley y en el plan universitario la dotación a la universidad será acordada por el gobierno para

en el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma

previa audiencia de la universidad e informe

uriarte sailburuak ere interpelazioa azaldu zuen hitz hauekin en el caso de la universidad pública de la upv

un modelo de financiación suficiente para el cumplimiento de sus finalidades

es debatir sobre el futuro de euskadi por eso desde elkarrekin podemos consideramos que invertir en educación

el futuro de calidad que se merece si bien para conseguir la reactivación económica y crear empleo digno orientado hacia un nuevo modelo productivo y de consumo responsable es necesario apoyar la innovación e implementar políticas de

y apoyar significa ofrecer en este caso a la upv los recursos que necesita es cierto que el señor lehendakari el pasado catorce de septiembre en la apertura del curso académico de la upv mostró su compromiso de mantener a euskadi como polo de innovación y nombró como uno de los retos el impulso de innovación y planteó

el cinco por ciento de presupuesto destinado a esta materia

encontramos en la presentación de los presupuestos el siguiente texto en el capítulo de la enseñanza superior y de la investigación en dos mil dieciocho se mantendrá el esfuerzo inequívoco de apoyar el avance hacia la excelencia del sistema universitario vasco que recibirá un total de trescientos diecinueve coma siete millónes de euros reforzando

e investigación planificadas que si lo comparamos con los presupuestos pasados podríamos pensar que efectivamente se da este incremento pero analizando capítulo a capítulo que dicho incremento es irreal o no cumple al menos para la universidad pública además la evolución de los presupuestos de la upv no muestra este compromiso

sigue estando muy lejos del dos mil diez de hecho tal y como se recogen la justificación

de la upv como la actual rectora continúan demandando más presupuesto porque si no no se podrá ofrecer a la sociedad vasca el servicio que necesita

gobierno a que la universidad sea palanca de cambio para esto

gestores de la universidad pública vasca porque esta demanda no es nueva ya que el rector iñaki goirizelaia en la comparecencia que ofreció en la comisión de educación el pasado mes de febrero

confirmó que no se habían cumplido los objetivos del plan universitario dos mil once dos mil catorce no pudiendo responder así a las necesidades de una universidad que aspira a la excelencia en los ámbitos de la formación y la investigación el plan universitario dos mil quince dos mil dieciocho que está en vigor y ya ha pasado su ecuador durante este curso académico y veremos el grado de cumplimiento de los objetivos sin embargo el camino se hace andando y aunque se disponga de un gran plan universitario

acompañado del presupuesto que necesita es por ello que nos parecía correcta la iniciativa presentada por eh bildu en la que se propone diseñar una planificación detallada para analizar las necesidades de la upv ehu y poder proceder a estabilizar sus presupuestos antes de determinar los presupuestos del año que viene

con representantes de estudiantes personal docente investigador personal de administración y servicios y la dirección de igualdad de la upv

con este grupo en que de momento se cumpla la ley así mismo cambiamos el orden de los puntos planteando para mostrar que veíamos más oportuno

y en segundo lugar dotarlas de presupuesto que necesita por eso hablábamos de instar al gobierno a que de cara al año que viene incremente el presupuesto de la upv al menos un cinco por ciento por último desde elkarrekin podemos consideramos que la educación y la investigación necesitan un marco estable de financiación

más allá de una legislatura parlamentaria y tal y como incluimos en nuestro programa electoral consideramos necesario hoy más que nunca impulsar un pacto por la ciencia y la innovación que promueva un gran acuerdo con todos los agentes y los actores sociales para asumir responsabilidades y proponer futuras mejoras de una manera coordinada consensuada e independiente de los cambios políticos la política científica y de innovación debe ser considerada

gracias presidenta hoy debatimos una moción

relativa a las intenciones del departamento de educación en relación con las necesidades de recursos económicos y de otro tipo que en área de investigación ha planteado la upv para nosotros la universidad

y tiene que ser uno de los ejes centrales en la construcción de un país el eje de la sociedad civil la gran mayoría de los profesionales que hoy en día tenemos y que tendremos en un futuro saldrán precisamente de las universidades de los ahora denominados grados anteriormente licenciaturas que es la propia universidad quien ofrece y oferta esos profesionales de lo que estamos hablando son los que posteriormente lideran y seguirán liderando las empresas y la sociedad vasca del futuro

para que la financiación mejore y para que la upv en este caso que es lo que a nosotros nos repercute y de la que estamos hablando

tenga el papel que le corresponde y le debiera corresponder en otros debates lo ha mencionado también la señora larrion se ha comentado el ranking de shanghái y lo cierto que hoy es una oportunidad para citar de nuevo este tema

es cierto que en el informe de dos mil dieciséis nos situamos entre el cuatrocientos y quinientos en el puesto del ranking de las mejores universidades del mundo

un poquito más arriba eso demuestra que hay que seguir trabajando desde las instituciones para obtener una mejora de la puntuación y escalar puestos en este ranking

en su docencia en su investigación y en cada ámbito que le competa como decía nos toca poner en valor el sistema universitario ese que tiene entre sus objetivos el desarrollo cultural económico y lingüístico de la sociedad

cuando argumentan que eso solo se puede conseguir si nuestro sistema es fuerte y rico y para ello es fundamental la intervención de la administración el futuro de euskadi

y sobre todo en el ámbito universitario cuando se forman a las personas con estudios superiores porque como he dicho al principio son y serán

e instituciones vascas pero por desgracia no siempre la calidad educativa se mide en euros

porque hablar de una cuantía exacta dándole un valor y marcando un porcentaje es en lo que no estamos del todo de acuerdo porque se puede ser más como se puede ser menos partiendo del presupuesto marcado

un cinco por ciento que es lo que viene a defender la iniciativa propuesta el presupuesto se mide también en función de la calidad del mismo y sobre todo de la estabilidad que este tenga por eso defendemos en la enmienda que ese presupuesto se continúe adecuando y evidentemente con perspectiva de mejora en lo que estamos conforme y nos parecería lo más adecuado sería que se cuantifijase se fijase una cuantía fija en los presupuestos que no varié cada año

dedicado a la upv algo sobre lo que también hicieron especial incidencia

eso es lo que defendieron que haya un presupuesto estable tanto o más que el anterior una vez que se fije en el presupuesto

y que esa cantidad aumente será bienvenida desde luego sea cual sea ese incremento con lo que no estamos de acuerdo es que en el porcentaje del presupuesto haya ido

porque evidentemente a una buena planificación le viene estupendamente un buen presupuesto para llevar a cabo muchos retos que la propia universidad y el equipo de gobierno

como por ejemplo la importancia de la internalización lo que tiene que ver con mejorar las colaboraciones entre otras universidades así como la relación entre otros países para poner a la universidad en el lugar que le corresponde así como invertir en investigación y desarrollo como ya está haciendo nuestra universidad

y el conocimiento otro de los aspectos que a nosotros nos parece importante para que la universidad del país vasco tenga una posición lo más relevante posible y que no tiene en este caso que ver

porque entendemos que introducir el inglés y que el inglés esté presente junto con el euskera y el castellano en la universidad abre oportunidades a los alumnos y para ellos trabaja la universidad del país vasco para los alumnos y para la sociedad donde van a vivir y es evidente que el trilingüismo introduce un factor añadido

nos parece importante por tanto ofrecer a nuestros alumnos un futuro que esté cargado de mayores oportunidades y que se refuercen también los dos idiomas vehiculares porque entendemos que el inglés facilita y abre las puertas que los alumnos necesitan nos hubiera gustado como a todos que la financiación pudiera ser mayor de lo que recoge el proyecto de presupuestos pero nos parece que sobre todo lo importante es que estos se vayan adecuando a las necesidades que vaya teniendo la universidad y sobre todo
que se garantice para la misma un marco estable para el futuro muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

para nuestro grupo la financiación de la red universitaria vasca es fundamental como también lo es y sin lugar a dudas

para ello creemos fundamental en este debate entender y conocer cómo se financia la universidad del país vasco y esta financiación sin ir más lejos viene explicada y pormenorizada en la ley del sistema universitario vasco

del sistema y allí podemos identificar tres tipos de aportaciones directas que recibe en este caso la universidad del país vasco como son

por otro lado tenemos la aportación complementaria es decir los contratos programa que varían en función de los objetivos específicos del departamento competente en materia de universidades en cada momento

y por último tenemos los créditos precisos para dotar al programa

igualmente en esta ley se recoge también que los presupuestos de la universidad del país vasco se nutrirán además de por la aportación a cargo de los presupuestos

generales de euskadi por los demás ingresos de derecho público y privado previstos como son por ejemplo los precios públicos o los precios por enseñanza así como también los contratos con otras entidades o personas físicas que se pudieran dar por parte de la universidad por otro lado tampoco podemos obviar la financiación que llega a la universidad del país vasco a través de otros programas

tales como la aportación de los grupos de investigación los programas de movilidad las becas generales pre y postdoctorales las subvenciones para organizar congresos así como otros programas que fortalecen el proyecto de la universidad pública tales como la aportación del dipc

la convocatoria del programa berc a estos programas hay que añadir también los que se gestionan a través de otros departamentos del gobierno vasco

obviar y entre los que hay que destacar aquellos que parten de y son gestionados por el departamento de desarrollo económico e infraestructuras encabezados y a través del plan vasco de ciencia tecnología e innovación o también los asociados al departamento de sanidad como digo estos son los programas principales pero no debemos olvidar que no hay un solo departamento de este gobierno que no colabore activamente y financie acciones y programas de la universidad del país vasco ya sea a través de cátedras

etcétera es por ello por lo que tenemos que dejar claro que a lo que aporta directamente el departamento de educación a la universidad del país vasco hay que añadirle muchos otros programas que teniéndolos en cuenta en su conjunto

sin ir más lejos y comparamos la financiación de la universidad del país vasco con la de otras universidades públicas del estado vemos cómo nuestra universidad pública es con diferencia la mejor financiada de su entorno es destacable cómo la financiación pública de la upv por parte del gobierno vasco está muy por encima de la de otras universidades públicas de referencia como pueden ser las catalanas o las

que hemos vivido en estos últimos años este gobierno ha seguido haciendo un esfuerzo relevante en relación a los presupuestos que el departamento de educación a la universidad del país vasco en este sentido creemos que el gobierno vasco a través del departamento de educación está gestionando correctamente y apoyando económicamente a la universidad pública

el plan universitario dos mil quince dos mil dieciocho y los criterios financieros que en el mismo se establecen quiero destacar aquí cómo otras comunidades cercanas por ejemplo navarra han dado paso a este tipo de acuerdos de forma muy reciente por lo que podemos decir que somos pionero y referente de otras comunidades y países europeos en este ámbito

ya que se está desarrollando en un periodo socioeconómico totalmente distinto al que había habido anteriormente en el que actualmente la disponibilidad presupuestaria es limitada y de crecimiento

es por ello por lo que los recursos que se comprometen en el plan para este periodo dos mil quince dos mil dieciocho y las actuaciones que se prevén apoyar deben estar basadas en criterios de eficiencia eficacia y sostenibilidad en definitiva se trata de gestionar de manera

el avance del sistema universitario vasco sobre la base de lo hecho hasta ahora que no es poco en concreto si acudimos al cumplimiento del plan vemos que el gobierno ha hecho esfuerzos sostenido en la aportación ordinaria y también

de los recursos asociados a programas competitivos gestionados por la dirección de investigación por lo que recibe cantidades sustanciales asociadas a los objetivos de gobierno en este ámbito

política científica europea promueve la competencia como base para la consecución de fondos económicos asociados a programas de investigación esta política requiere además definir proyectos y presentarse a convocatorias y es una política que coincide completamente con la política científica vasca y que por tanto es indispensable mantener por el bien de la propia universidad pero no solo eso creemos que de cara al próximo plan el plan dos mil diecinueve dos mil veintidós cuya elaboración comenzará en breve se debe primar el objetivo firme de progresar hacia la excelencia

un objetivo que debemos ayudar a perseguir a través de la elaboración de un plan ambicioso en este ámbito que persiga objetivos cuantificables evaluables y también factibles que estén acompañados de una financiación acorde a los mismos en las tres modalidades que he comentado al principio de mi intervención así como

es por eso por lo que creemos que más allá de los porcentajes las cifras y otras cuestiones y debates puntuales debemos quedarnos con el compromiso firme que ya se recogía en el plan universitario actualmente en vigor

socialista de forma que la financiación de la universidad del país vasco continúe adecuándose a las necesidades y sus objetivos reales de la universidad pero no solo eso ya que además prevemos e instamos al gobierno vasco a que la elaboración del próximo plan el plan dos mil diecinueve dos mil veintidós

pero también del resto de universidades que componen nuestro sistema de forma que en definitiva se consiga mejorar el mismo eta besterik gabe ezkerrik asko eskerrik asko

así como la enmienda que han firmado los grupos eh bildu y podemos lo primero que nos llamó la atención

a estas alturas del curso creemos que estas peticiones de aumento de presupuesto debieran ir más bien vía enmienda al presupuesto de dos mil dieciocho que a una proposición no de ley porque aumentar el cinco por ciento pues nosotros no décimos que no pero décimos para qué dónde

voy a referirme a los datos del último presupuesto que tenemos aprobado que es el del año pasado vamos el de este año dos mil diecisiete cuatrocientos tres millónes un cinco por ciento si no me equivoco serían veinte millónes más de acuerdo es posible

por tanto creemos que este tipo de aumentos se debiera hacer más bien vía enmienda al presupuesto pero luego hay otra cosa que casi da

decirla y es que nosotros estamos aquí para pedir al gobierno

la sociedad porque nosotros representamos a los ciudadanos y aquí hemos trasmitido

como lo de la rectora ambos piden más dinero

pero también estamos aquí para transmitirle al gobierno

al gobierno para que el gobierno se las haga a la universidad y por qué digo esto bueno nosotros creemos que hay que hacer un estudio

de qué pasa con nuestra universidad y qué le piden los ciudadanos a nuestra universidad

al gobierno que le pida a la universidad este es un camino bidireccional bidireccional

excepto vía enmienda y que me digan exactamente en qué partida pero qué le piden los ciudadanos a la universidad pues yo creo que le piden excelencia

jóvenes vascos que salen de la universidad sean considerados excelentes este es el caso ahora pues mire esto cuesta decir cuesta decir porque parece que estás hablando mal

es la única forma de mejorar la situación entonces vamos a ver

e incluso del sistema universitario vasco incluyendo la universidad de mondragón la universidad de deusto de todo el sistema universitario vasco pero es que no somos una isla no somos una isla entonces vamos a ver qué pasa cómo nos consideran en el ámbito internacional y además respecto de las universidades

del ranking de shanghái vamos a leer qué otras universidades españolas cómo es el ranking de las universidades españolas primero pompeu frabra luego universidad de barcelona luego

luego autónoma de barcelona luego autónoma de madrid luego

luego santiago de compostela luego politécnica de valencia

luego ahí llegamos nosotros la universidad del país vasco y por detrás de nosotros está la universidad de valencia

fundación para el conocimiento y desarrollo los datos que les he dado antes son del diecisiete estos son del dieciséis que dice que la upv

dedica por alumno de todas las universidades en españa exactamente

euros y la que también tiene menores tasas mil doscientos cuarenta y tres euros datos de dos mil dieciséis

toda la ciudadanía vasca está haciendo una gran inversión en la universidad

al gobierno para la universidad haciéndonos portavoces de los rectores es también lo que le pedimos al gobierno que le pida a la universidad creo que haciéndonos portavoces de los ciudadanos mire les voy a dar otro ejemplo la universidad de granada que está la tercera en el ranking de dos mil diecisiete la universidad de granada tiene

profesores nosotros tenemos cinco mil setecientos nueve no les voy a decir que el doble

con dos tercios o menos de nuestros profesores atienden

alumnos nosotros con un tercio más atendemos

que la universidad de granada y como ustedes saben bien

donde nosotros el año pasado era cuatrocientos tres millónes

es trescientos noventa y uno millónes parecido pero para atender a muchos más alumnos

una en la que nosotros quedamos mejor del número

es la especialidad de ingeniería tecnología y ciencia de la computación

estamos entre ciento cincuenta y uno y doscientos bueno saben dónde queda la universidad de granada con estas cosas que les he explicado es la número cuarenta y cinco saben qué universidad es la que tiene anualmente un mayor número de patentes la universidad pública de valencia señores

adelante y despegue y chute qué hay que poner el cinco por ciento más pues de acuerdo ahora eso sí vía enmienda y díganme dónde pero lo que tenemos que hacer es un estudio

muy serio para saber por qué

siendo la comunidad autónoma que gasta más dinero por alumno

de todo el país

la décima en el ranking de shanghái que seguimos en el ranking de shanghái por los pelos que estamos en el puesto cuatrocientos noventa y dos

que en el año dos mil doce estábamos en el puesto trescientos cuarenta y pico y empezamos a bajar bajar y bajar y en el año dos mil quince subimos subimos bastante en el dos mil dieciséis volvimos a bajar

pero no hemos llegado a los niveles del dos mil quince esto no nos tendría que hacer reflexionar como sociedad por eso nosotros vamos a votar

que son los que sostienen al gobierno pero no lo queremos apoyar para pasar y dar una larga cambiada no les pedimos les suplicamos por favor que se lo tomen en serio que se lo tomen en serio

y que hay que compaginar lo que piden los rectores que me parece bien con lo que pide la sociedad vasca todos los que estamos aquí yo creo

conocemos a chicos y chicas con unas notas excelentes excelentes que se están teniendo que ir a trabajar fuera tenemos que crear ese verdadero caldo de cultivo que cree empleos que nos haga

no lo es por eso no hemos querido tampoco unirnos a la enmienda es una verdadera no voy a decir súplica porque suena un poco mal

una verdadera petición de que se lo tomen en serio acuérdense los que más gastamos por alumno en toda españa y estamos en el puesto décimo y estamos arañando

de el índice de shanghái esperamos confiamos en que de verdad se lo tomen tan en serio como pedimos muchas gracias

porque cuando comparamos también la evolución de gasto vemos que en plena crisis económica fue con la consejera celaá y con pedro luis uriarte como director de universidad sé el esfuerzo que se hizo y hasta se lo he notado en sus palabras

seguro que alcanzamos este tipo de acuerdos con lo cual creo que ahora es esclavo de sus acuerdos lo cual entiendo perfectamente pero creo que los que soñamos con una universidad de otra manera y con otra forma de hacer lo público tenemos un futuro por delante

volvernos a encontrar señora bengoechea al margen de algunas cuestiones algún dato de los que ha dado es incorrecto sin más el número actual y la cifra que se dio a principio de curso por ejemplo de profesores en la universidad en estos momentos

pero algún dato puede ser incorrecto como todos presentamos alguno incorrecto tampoco iba a decir más pero bueno las cifras no son exactamente esas sin embargo

es directamente lo que se ha pedido desde la propia universidad

también voy a decir sus palabras este el de este año sin duda no es sin duda el presupuesto que necesita la upv seguiremos trabajando para que esta situación mejore

ni competir con solvencia en un contexto universitario cada vez más exigente

para llegar a los acuerdos necesarios que permitan el próximo año encontrarnos en una situación más favorable por eso lo hemos traído ahora lo pedían para el siguiente año

discursos que ellos han dado la financiación de la universidad vasca debería aumentar al menos un cinco por ciento

la financiación de la upv que iría en principio destinada a apartados como la investigación porque la ley de estabilidad presupuestaria del gobierno impide aumentar plantilla y redistribuciones en cualquier caso seguro que no solo son más que capaces de decirnos en qué va a gastar el cinco por ciento

para la paga el aumento que se tiene que dar del uno por ciento a los funcionarios pero creo que si ese es su interés por saber a qué dedicar el cinco por ciento hay

que sobre todo si nos lo hubiera dicho también antes de este momento la podríamos haber relatado y trabajado porque desde luego las necesidades de la universidad de la upv van bastante más allí del cinco

álvarez yo le invito a usted por cómo además lo ha dicho a que coja el documento de presupuestos que nos han presentado y que coja usted el del año dos mil diecisiete le voy a decir además qué partida vaya

tres y lea que planteaba para el año dos mil diecisiete

y que pone entre paréntesis crédito comprometido

y pone veintidós coma cincuenta y cuatro millónes de euros y ahora vaya a esa partida en el proyecto de presupuestos de dos mil dieciocho y vea cómo el gobierno ha bajado del veintidós coma cincuenta y cuatro al veinte coma novecientos catorce que haga exactamente lo mismo con la setenta y uno millónes ochocientos uno mil dos

y un crédito comprometido para el dos mil dieciocho de nueve coma doce lea que ahora pone siete millónes

precisamente usted que ha hablado de qué tipo de aportaciones son

en base a objetivos vea cómo lo que se decía desde el gobierno el dos mil diecisiete el dos mil dieciocho se ha disminuido esas cantidades claro que esas son las formas de dar la financiación a la universidad del país vasco es que están bajando es que están bajando

que dice respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento del cuatro coma tres por ciento página doscientos cuatro de esta partida lea cómo para la universidad del país vasco

de eso estamos hablando precisamente de los acuerdos en el plan universitario que tenía el gobierno con la universidad del país vasco y que se está incumpliendo
igual esos no se los había leído pero eso es lo que estábamos reclamando eskerrik asko eskerrik asko larrion anderea

bueno contestando un poco al señor pastor en referencia del cinco por ciento un poco lo ha mencionado ya

la rectora pedía un cinco por ciento y fue el lehendakari

palabras textuales para dar un pulso a la innovación

y del actual lehendakari nuestra sorpresa es cuando

por el consejero de hacienda y haciendo números

un cuarto de este presupuesto es para la upv el resto entendemos que son para las enseñanzas universitarias pero desde luego este cinco por ciento

no es tal de ahí nuestra preocupación y de ahí

la iniciativa de eh bildu al señor álvarez le diré que vamos a seguir intentando en ser referencia no sea que nos durmamos en el inconformismo y nos quedemos en cifras como las que mencionaba la señora rectora

tendremos oportunidad no obstante de presentar todas nuestras dudas el martes en la comparecencia de la consejera con el consejero de hacienda para que aclaren

macazaga que efectivamente ustedes plantean un porcentaje concreto de subida es verdad probablemente no sea

insistieron en ese tema pero insistieron tanto o más en la estabilidad financiera de la upv porque no hay universidad ni la upv ni ninguna otra que pueda hacer ninguna planificación

mínimamente estable digo tanto o más importante que la cuantificación de la misma

como usted decía en su intervención estamos en el momento oportuno ahí estará la decisión política la oportunidad y las ganas de llegar o no a un acuerdo presupuestario nosotros hemos invitado públicamente a todos los grupos lo volvemos a reiterar a que vía enmiendas ustedes puedan o intenten por lo menos mejorar

del sistema universitario vasco en este caso de la financiación de la upv eskerrik asko pastor jauna

que cuando la señora larrion ha comentado las declaraciones de la señora rectora de la universidad del país vasco

que haya terminado la frase en el cinco por ciento porque sí que es verdad que leyendo la frase completa dice el cinco por ciento en este mandato por lo tanto

la financiación de la universidad del país vasco de forma que continúe aumentando y

señora larrion no me he equivocado lo que

los datos que le he dado a usted son del año dos mil diecisiete excepto uno

que es de dos mil dieciséis y que hace referencia a los números de dos mil quince

que son correctos y después de todas las intervenciones que hemos escuchado nosotros desde luego vía enmienda vamos a intentar mejorar la dotación

porque escuchamos atentamente tanto la intervención

pero seguimos insistiendo en que este es un camino bidireccional aquí estamos pidiéndole al gobierno

haciéndonos portavoces de los rectores

y nosotros creemos que tiene que haber un nivel de exigencia razonable prolongado en el tiempo escalonado si se quiere pero que los resultados que actualmente comparativos que tenemos de la upv no se compadecen con el esfuerzo que hacen los ciudadanos lo que yo les decía más inversión por alumno

de españa y somos los décimos nos agarramos para no caer fuera del ranking y además tenemos uno de los presupuestos mayores en general

para pedirle que así como tiene que atender

también tiene que trasladarle las exigencias de la ciudadanía no somos

tenemos comparativas muy cercanas y la gran comparativa internacional que es shanghái y no estamos

no lo estamos teniendo ya le digo la universidad pública de valencia

por qué no vamos a ser nosotros si estamos invirtiendo más dinero por qué no debiéramos serlo entonces

vamos a votar a favor de la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno pero trasladamos transmitimos esa

representado por la señora consejera que no solamente atienda a las peticiones de la universidad lo cual hay que hacer

en ese sentido sino también transmita las demandas de la ciudadanía que no pueden estar satisfechas con los resultados
que en estos momentos obtiene la universidad pública del país vasco muchas gracias eskerrik asko